plan estrategikoan durante estos tres años de legislatura

de un cambio radical de estructura organizativa en la ertzaintza elaboraron un ambicioso plan estratégico

que ha enmarcado las posteriores decisiones en materias organizativas y operativas incluyendo el mencionado cambio de estructura

en el que desaparecida la amenaza de eta y las necesidades de protección y autoprotección que ello generaba

el espíritu de una policía integral nacida del pueblo y de su voluntad de autogobierno para el pueblo y cercana un espíritu fundacional

sociedad vasca en términos de cercanía investigación e inteligencia policial desde la eficacia la eficiencia y la mejora continua

volvemos a escuchar voces sindicales que insisten en los mismos temas de caos e ineficiencia que les escuchábamos antes de la de elaboración del mismo voces por otra parte señora consejera

y que han afectado a todos los consejeros que le han precedido en el cargo voces que ahora insisten además en la falta de recursos

que era precisamente una de las áreas de mejora que pretendía su departamento de hecho ayer nos encontramos con la noticia

con el fiscal superior de euskadi y las posteriores declaraciones de este diciendo que pedirá explicaciones al departamento de seguridad sobre investigación

que pedirá explicaciones al departamento de seguridad calificaría de sorprendente la noticia si no fuera por la conocida costumbre del señor calparsoro de meterse en camisa de once varas en materia que se escapan abiertamente a sus competencias

entiendo debieran también escapar de sus ocupaciones salvo que descubramos ahora que la fiscalía del país vasco tiene competencias en materia de auto organización interna

y las voces discordantes que hablan de carencias en determinados servicios señora consejera nos gustaría respuesta a las siguientes cuestiones podemos dar por culminado ya el dimensionamiento de efectivos de las distintas unidades de la ertzaintza que se proyectó en el plan estratégico dos mil dieciséis y ha hecho el departamento en este concurso de traslados previsión suficiente para cubrir todas las necesidades en las distintas unidades y servicios

para empezar por lo más mediático señalar que el fiscal superior del país vasco tiene en su mano la posibilidad de trasladar cuantas cuestiones y consultas considere oportunas

instrumento de coordinación que se creó precisamente a instancias de la adjudicatura y derivado del plan general de seguridad pública

en estos tres años efectivamente hemos realizado cambios muy importantes

cambios organizativos y de dimensionamiento pero sobre todo de adecuación a las características y a las necesidades del modelo policial

general de seguridad pública de euskadi y también que la sociedad vasca demanda el ensamblaje entre el nuevo modelo policial establecido

y los cambios organizativos que ello conlleva

implantar pero es evidente que es un recurso fácil de eslóganes sindicales pero los cambios

cada unidad tiene la dimensión que se ha considerado necesaria

adecuada para los servicios y las funciones que desarrolla con relación al área de investigación que usted me preguntaba hace tres años el ochenta por ciento del personal

y a elaborar los atestados y únicamente el veinte por ciento únicamente el veinte por ciento se dedicaba a realizar la investigación de casos actualmente esto ha cambiado el cincuenta por ciento de los ertzainas del área de investigación

esto nos ha permitido dar un salto cualitativo en la búsqueda de eficacia y de calidad del servicio ese servicio que la ertzaintza ofrece a la sociedad vasca en materia de prevención y la reducción del índice de delitos desde la investigación

más eficaces en este tiempo noventa investigadores se están formando como expertos se han formado como expertos en inspecciones oculares algo que consideramos que es la base para realizar una buena investigación sobre todo de los delitos más graves

actualmente en estos meses se está desarrollando un curso de formación de investigadores de especialización en investigación en la academia de arkaute y producto del concurso de traslados y por tanto de la libre elección

más cercano a su domicilio se ha generado algunos huecos

y está en vías de solución porque son temas que estaban previstos y analizados porque el origen es sobradamente conocido la priorización de la antigüedad

a la hora de elegir plaza los esfuerzos del departamento de seguridad están centrados por tanto en la consolidación de este modelo policial un modelo

en términos de más cercanía más prevención y más prevención desde la investigación y desde la inteligencia policial eskerrik asko eskerrik asko

un doble objetivo primero la corresponsabilidad parental desde el momento del nacimiento y de hecho hemos procedido a una ampliación del presupuesto dos mil dieciséis en este sentido

en línea con la propuesta de emakunde en su sexto plan de igualdad y ya que hablo de emakunde traigo también a colación lo que fue

la guía que emakunde editó ya en el año dos mil ocho

la nueva masculinidad que creo que es una guía de referencia

para el fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral y como le he dicho en euskera

integral para avanzar en unos objetivos que compartimos plenamente eskerrik asko

señora etxeberria la equiparación avanza partiendo con claridad

no podemos obviar la legislación básica y en este sentido exigimos la competencia en materia de seguridad social necesaria para adoptar medidas de carácter general

y quiero recordar que el régimen de permisos está acordado con los sindicatos desde el año dos mil diez y ahora vamos a presentar el primer plan para la igualdad en la administración general incluyendo medidas en el ámbito de la conciliación somos conscientes de que debemos evitar cualquier discriminación con el sector privado por lo tanto marco general y también no discriminación de lo que es la función pública con el sector privado hau guztia

buenos días lehendakari consejeros consejera señorías bien lo primero que quiero hacer es

nuestra absoluta repulsa a los provocadores que utilizan a los ciudadanos pacíficos para reventar actos públicos y vale esta repulsa para los extremistas de otras tierras y para los de la nuestra los autóctonos que siempre encuentran excusas y terreno abonado para manifestar y justificar su violencia vaya también por delante nuestra solidaridad con los bilbaínos que tuvieron que padecer a estos energúmenos y a los comerciantes y hosteleros que se vieron afectados y que atendieron a quienes estaban siendo agredidos o amenazados incluso comprometiendo su propia integridad y vaya sobre todo nuestra solidaridad

una vez más superados por una planificación claramente insuficiente que puso en peligro la seguridad de los ciudadanos y la suya propia

es recurrente esta denuncia de los profesionales de la seguridad como es recurrente también que la organización de determinados dispositivos no solamente arregla

produciendo y causando otros daños hace hoy un año

sufrieron en vitoria en el aniversario del tres de marzo antes había sido el foro mundial y antes había sido otro partido de fútbol concretamente el euskadi bolivia pero la respuesta de su departamento consejera siempre ha sido la misma que todo estaba bien

y además no podemos dar todo por hecho porque si diéramos por hecho no estaríamos aquí haciendo una pregunta retórica ni esperando una respuesta que no fuera otra cosa que nada o ninguna por eso

qué medidas va a tomar para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía vasca y evitar este tipo de incidentes gracias

eskerrik asko mahaiburu andrea mire señora gallastegui la comisión contra la violencia en el deporte y las actitudes xenófobas y racistas

justo pocos días antes de que la propia dirección de juego y espectáculos del departamento

impulsara una campaña de concienciación contra la violencia en el deporte campaña que contó con la aprobación y el apoyo y también el compromiso explícito de los diecisiete clubs de fútbol de primera y segunda y de los tres clubs vascos de baloncesto que están en la acb

justamente coincidiendo con la circunstancia de que todos los clubs jugaban en casa

con el decálogo de buenas prácticas emitimos spots en los videomarcadores emitimos cuñas de radio anuncios de prensa carteles en fin la campaña estuvo en marcha el objetivo de la campaña sobre todo era poner en valor la responsabilidad personal frente a comportamientos y actitudes violentas en el ámbito deportivo preguntaba usted señora gallastegui qué medidas va a tomar el departamento de seguridad para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía

pues mire sobre todo medidas preventivas esa es la vía en la que hay que insistir desde todos los ámbitos también desde los operativos policiales en los partidos de fútbol

prevenir para evitar y seguiremos en esa línea de trabajo concienciar para prevenir y prevenir para evitar eskerrik asko beltrán de heredia

es que no me ha respondido usted porque en realidad lo que está claro es que la previsión que hizo los mandos de la ertzaintza de lo que iba a ocurrir falló absolutamente

y hay una cosa que llama la atención y es que tenemos un relato de que hechos ocurrieron precisamente porque había gente había periodistas que estaban viéndolo

hay un relato periodístico de profesionales que estaban en la cita del parque de doña casilda y que acompañaron a los provocadores hacia la zona de

acompañando ninguno también hemos visto millónes de imágenes

al ambulatorio hay grupos que se enfrentan que se lanzan sillas de las terrazas y

y no hay ni un solo ertzaina hay pruebas

donde los trabajadores de un restaurante tienen que rescatar a una persona que estaba siendo agredida y allí

despliegue policial enorme en las inmediaciones de san mamés pero todo el recorrido que todo el mundo ve cómo estamos garantizando la seguridad de la ciudadanía que anda por la calle que hay un motón de energúmenos obviamente lo sabemos pero sabemos es su labor consejera

el resto de las personas que van por la calle puedan ir con cierta seguridad

la pregunta que se hace todos los ciudadanos es cómo se puede permitir cómo se puede permitir que

y la ertzaintza no esté controlando eso había ciento cuarenta y cuatro efectivos de la ertzaintza si no me equivoco consejera

señora gallastegui a tenor de su pregunta y de las preguntas que voy a contestar hoy en esta sesión de control parece que toda la problemática de la violencia en el deporte
se centra exclusivamente y digo exclusivamente en el control del orden público

el número de agentes destinados a la seguridad en este partido de alto riesgo el plan de seguridad se elaboró con antelación suficiente con información contrastada y con criterio profesional tanto en lo preventivo como en lo relativo a la ejecución

a pie de calle cumplieron con el trabajo encomendado y planificado pero es verdad es verdad algunos solo algunos de los aficionados del olympique de marsella

en un breve espacio de tiempo se encontraron e intentaron armar una batalla campal que la actuación de la ertzaintza evitó la actuación de la ertzaintza

y vamos a seguir trabajando por mejorar nuestros servicios evidentemente

para que esta parte minoritaria de la afición deje de alentar planificar

y que hoy debería preocuparnos bastante más por qué se pone el foco exclusivamente en la actuación policial y no sobre

este tipo de incidentes eskerrik asko eskerrik asko beltran de heredia

muchas gracias vaya de antemano la condena a los violentos y nuestra solidaridad con los comerciantes con los ciudadanos y con los propios agentes que tuvieron que sufrir el caos que fue bilbao el jueves pasado y fue un caos porque la consejería de interior quiso que fuera

trescientos eran ultras y lo sabían y aquí está la prueba de que lo sabían y a pesar de ello

de ese calado no se hizo no se hizo había orden de no actuar de no utilizar la fuerza única y exclusivamente utilizar medidas de contención y eso suponía defenderse solo si atacaban a los propios agentes

también cómo eso aparece por escrito ello trajo consigo que los ultras camparan a sus anchas que se derribaran contenedores que se lanzaran sillas

navajas ante la mirada y la inacción por parte de los agentes los ciudadanos pasaron situaciones de miedo y se preguntaban dónde

que se introdujeran bengalas con lo que supone de riesgo y con lo que supone probablemente de multa al equipo que además tiene que pagar por la seguridad que se desplegó

el pasado jueves se puso en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes se vio una imagen deplorable una imagen deplorable de bilbao

un conjunto de hombres y mujeres absolutamente capaces profesionales pero que aparecieron como una policía de playmobil como una policía desbordada superada y todo ello

dirigida que es de forma nefasta y es que no es nuevo

se estrenaron ustedes en anoeta con incidentes y agentes heridos

pasó en el foro económico en todos ellos la policía parece absolutamente desbordada sin actuar dando una imagen que no es la que se corresponde

por todo ello le quiero preguntar señor lehendakari qué valoración le merece la organización del operativo de la semana pasada

de estos asuntos no es hora de tomar medidas no cree que es hora de reordenar el departamento y sustituir a los responsables del mismo

no sé cuál es la imagen que tiene que dar la policía para ustedes

me pongo en la piel de las personas que en ese momento sufrieron los acosos de los violentos y sé lo que pudieron sufrir

y ha vuelto a ocurrir en bilbao algunos aficionados se empeñaron en encontrarse y un grupo reducido acabó encontrándose en actitud provocativa y violenta

usted lo sabe pero lo cierto es que las furgonetas de la brigada móvil desplegadas y los responsables directos del operativo controlaron la situación en cuanto se iniciaron los incidentes

que los incidentes entraran en una espiral de acción reacción con el riesgo de extenderse esos incidentes a otros lugares de bilbao y también de generar más daños a las personas señora llanos si usted no insistiera tanto en avalar las tesis de los sindicatos

hoy podría estar seguramente valorando que la situación estuvo bajo control y que el operativo policial previsto cumplió con uno de sus principales objetivos resolver in situ situaciones de riesgo con la máxima celeridad posible

una pena que no me haya contestado usted señor lehendakari porque realmente es difícil entenderse con alguien para que la solución de los problemas sea repartir unos dípticos para quien

ni ha leído un periódico ni tan siquiera se ha preocupado en todas las personas en todos los comerciantes que pasaron miedo en preocuparse por su situación porque realmente

y es lo que sufrieron los bilbaínos y lo sufrieron por su ineptitud señora consejera por su ineptitud porque a usted lo que le prima es la imagen y ustedes dicen qué imagen quieren dar

y aparecer como una policía desbordada desarbolada que no es capaz cuando

lo sería perfectamente si tuviera al frente a una persona y unos responsables capaces pero no lo tienen por eso mi pregunta iba dirigida al lehendakari yo creo que es hora porque además de esto

no hay más que ver la unanimidad sindical y las protestas todos los días a usted igual ya la fuerza de la costumbre hace que le parezca normal pero no es normal no es normal que lleven dos años

por eso yo le hacía la pregunta al lehendakari porque creo sinceramente que tiene que recomponer el departamento de arriba abajo empezando por usted

sabemos lo que ocurrió señora llanos sabemos lo que ocurrió cuándo cómo y por qué magnificar un minuto de imágenes

lo que no ocurrió por mucho que usted insista pero insisto me solidarizo con las personas que sufrieron el acoso de los violentos es desagradable y sobre todo es peligroso

cara todo estuvo bien y punto y cruz no hubo ni previsión ni capacidad de reacción ni criterio de actuación y punto vuelta a empezar pero las cosas no son así ni en esta profesión ni en otras muchas y le voy a dar un dato

se reunieron en la prefectura de la policía de marsella el prefecto de marsella el jefe de estado mayor de la seguridad pública el comandante en jefe un miembro del servicio de inteligencia dos comisarios del gabinete de la prefectura de la comisaria de marsella dos representantes del club de marsella

de los incidentes del partido de ida en marsella el trasvase de información ha sido constante como no podía ser de otra manera

en estos temas yo como consejera voy a seguir animándoles y también

que mejoren al máximo todos los resultados todos los servicios de seguridad que tengamos que cubrir evitar todo en cualquier incidente o cualquier altercado sobre todo cuando no hay voluntad explícita por las partes por causar y causarse daños es muy difícil y usted lo sabe

creo sinceramente señora llanos que eso es una

por mucho que usted quiera revestirlo de lo que quiera revestirlo una injusticia

actuó con planificación con proporcionalidad y con profesionalidad eskerrik asko beltrán de heredia

buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari un amigo ertzaina creo que resume

y los cambios que se han producido desde que usted señora consejera

todo lo que funcionaba mal sigue funcionando mal y aquello que funcionaba bien ahora funciona mal este es el resumen de la situación en la que se encuentra la ertzaintza

y su incapacidad para dirigirla tenemos a una policía en un conflicto sindical permanente una policía que se siente incapaz por falta de material

a la amenaza yihadista una policía con graves problemas de gestión interna como se ha demostrado a la hora de organizar unas elecciones

o con las comisiones de servicio y una policía que tiene

totalmente descapitalizada por falta de medios materiales y humanos señora consejera que se produzcan

eventos puede ser desgraciadamente algo demasiado habitual el problema es que en euskadi lo que viene siendo ya habitual es la incapacidad de la ertzaintza para hacer frente a esos altercados y para garantizar la seguridad de los ciudadanos

a la ciudadanía vasca no es educar a los locos que vienen de fuera a montar jaleo dentro

eso es lo que tiene usted que garantizar y lo que no ha garantizado hasta ahora por lo tanto en fin la pregunta era retórica le preguntaba si usted consideraba que

la correcta es evidente que no a la vista de los resultados por lo tanto la pregunta que yo le haga es si efectivamente usted va a cesar al director

eskerrik asko yo he leído los argumentos que usted expone en su pregunta señor maneiro y

que como se preveían alrededor de trescientos alborotadores hubiéramos tenido que poner otros tantos ertzainas y si hubiera previsto mil

de muchas horas de análisis de trabajo de decisión los responsables policiales

hasta las primeras horas de la tarde y alrededor de doscientos agentes desde las tres de la tarde hasta que finalizó el partido

además tanto por la mañana como por la tarde de refuerzos de seguridad ciudadana agentes de información tres agentes franceses especialistas en este tipo de eventos

para controlar los accesos y también el interior de san mames y veinticuatro más que acompañaron a la afición marsellesa desplazados con el olympique el partido era de alto riesgo

del partido de ida en marsella y el plan de seguridad organizado al efecto en bilbao fue proporcional mucho más amplio más planificado más continuado
que lo que es habitual en los partidos de futbol de primera señor maneiro eskerrik asko beltrán de heredia andrea maneiro jauna zurea da hitza

señora consejera usted me explica cuál fue la planificación y yo le pregunto por el resultado de esa planificación cuál fue el resultado de esa planificación

y no es la primera vez que ocurre son ya varias veces con lo cual se demuestra la incapacidad suya

para dirigirla correctamente y por lo tanto yo le pido su cese

incapacidad manifiesta demostrada durante todos estos años su dimisión ya ha sido pedida por varios sindicatos yo también se la pido hoy aquí mire señora consejera no pretendemos que usted trate de concienciar a los ultras que vienen de fuera eso es bastante complicado y además no es su labor no queremos tampoco que muestre su solidaridad con los ciudadanos vascos queremos que garantice su seguridad es usted la consejera del departamento de seguridad por lo tanto esa es su labor principal justo

insuficiente había antecedentes el partido era de alto riesgo estaban avisados y el olympique es el club que más ultras tiene entre sus aficionados europa estaban sobre aviso sin embargo actuaron de manera absolutamente lamentable aplicaron la política

el problema de no hacer nada es que algún día van a volver a repetirse en fin situaciones desgraciadas que hemos padecido en euskadi por culpa de su incompetencia y por culpa de la incompetencia del director por eso pido su dimisión por no cumplir el trabajo que tiene encomendado garantizar la seguridad de los ciudadanos

voy a seguir insistiendo señor maneiro el plan de seguridad previo y posterior

fue lo que los responsables policiales y de seguridad consideraron proporcional al evento y a sus circunstancias y también la ejecución la actuación policial

evitó mucho más que lo que ocurrió pero si quiere que le diga la verdad tampoco creo que ni usted ni yo misma seamos capaces de medir ni cuantificar ni siquiera de calificar

y cuánta más gravedad hubieran tenido los hechos que hubieran podido pasar si quienes querían enfrentarse y apalearse no hubieran tenido el control

los hechos de ese día usted me decía cuáles son los resultados pues le voy a decir una persona

por impacto de una botella tres ertzainas sufrieron lesiones leves nos consta que ya después de acabado el partido otra persona

denunció una herida por cortes en la rodilla

volcaron eso sí un contenedor de residuos sólidos en la calle

maría díaz de haro lo que afectó al retrovisor de un vehículo fracturaron el escaparate de un comercio en la calle doctor areilza y cuatro bares sufrieron daños en el mobiliario exterior en la calle

estas son las denuncias que hemos tenido estas son las denuncias de las que tenemos constancia en relación con aquellos incidentes le recuerdo también

seguidores del marsella por lo demás la afición marsellesa ese día hizo ruido mucho ruido

bengalas cortes de tráfico por aglomeraciones cosas que evidentemente molestan y molestan mucho pero lo cierto es que gran parte de esos mil doscientos aficionados

vinieron a pasarlo bien a disfrutar con su equipo a disfrutar también de la ciudad y así lo hicieron

la ciudad que hay que decir les acogió y la ertzaintza se ocupó también de la seguridad
de esas mil doscientos personas eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

dicha política nos ahoga y puede hacer que dos mil diecisiete sea presupuestariamente para el gobierno vasco

más demandas de políticas sociales más y mayores exigencias

y cumplimiento del déficit y todo ello con menos recursos necesitamos disponer de capacidad financiera para proyectos estratégicos y de innovación

y habla de la necesidad de un fondo para ello defizit muga

la vigente legislación laboral competencia del estado permite por tanto modalidades contractuales que carecen de estabilidad y duración en el tiempo lo que a su vez genera inseguridad y duración y falta de certeza en los trabajadores si a esa falta de estabilidad y duración se le suma

nos encontramos con una situación que nadie deseamos y por lo tanto queremos abordar de manera urgente y posibilista pero es evidente que este gobierno tiene sus limitaciones

la legislación laboral es competencia exclusiva del estado según establece la constitución mientras que la competencia de la comunidad autónoma de euskadi se limita a su ejecución usted sabe señora arrondo que dentro de nuestras propias competencias desarrollamos

para la creación de empleo que buscamos condiciones que mejoren el empleo de calidad programas plurianuales que incluyen planes locales y comarcales primeras oportunidades para jóvenes con contratos con prácticas incentivación a la contratación de mayores de cuarenta y cinco años

voy a hacer una mención al plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis que ha supuesto una inversión está suponiendo de setecientos setenta y cinco millónes de euros

el objetivo del plan de reactivación económica y de empleo va a suponer

empleos incentivados sabemos por lo que he explicado en varias ocasiones ante este parlamento que este plan de empleo

fomento de la economía local y comarcal apoyo al emprendimiento empleo juvenil formación para el empleo

como usted sabe no entra dentro de nuestras competencias la posibilidad de establecer cambios en la normativa como nos gustaría deseamos y reclamamos por otra parte también quisiera indicarle que el incumplimiento de la normativa laboral de contratación no solo es un mecanismo de precarización sino es también un fragante incumplimiento de la normativa vigente y por lo tanto perseguible y sancionable no es menos cierto que hay casos en los que llega a utilizarse y de hecho se utiliza para conseguir una situación contractuales extremas

estados de necesidad y en muchos casos indefensión de los propios trabajadores que no acuden a los organismos competentes de inspección

escasos pero necesarios para muchas familias estas situaciones son un fraude a la legalidad y a la moral tanto laboral como a la seguridad social situaciones que hay que combatir por la vía de los hechos

lo que podemos y que en ello estamos pero para limitar esta actuación ilegal irresponsable reprochable y sancionable no cabe sino la actuación inspectora por parte de este gobierno

a las denuncias que eventualmente se nos presentan hemos respondido a más de una pregunta parlamentaria en este sentido dando datos de la inspección sanciones

pero en este caso se trata de atajar no la precariedad sino actuaciones ilícitas mediante el despliegue de la potestad administrativa

una de las cuestiones que más preocupa por su generalizado impacto social constituye una prioridad política de primer orden necesariamente

porque ambas cuestiones no pueden ir disociadas sabemos que sigue siendo necesario seguir trabajando en problemas como el empleo el desempleo juvenil y el de la población con más edad con grave riesgo de convertirse en un colectivo de población parada de larga duración

disminuir se cronifique en el tiempo y aumente en su magnitud sabemos que esa estrategia debe además diseñarse con la máxima participación social

a todos que tienen un mayor conocimiento de la realidad y prospectiva de nuestro mercado de trabajo y en especial de la evolución previsible de nuestros sectores productivos

buenos días de nuevo señor lehendakari este martes asistimos a lo que algunos quisieran que se pareciese al rodaje de la segunda parte de la película invictus

y digo que algunos quisieran que se pareciese porque la historia dista mucho de ser la misma en ambos casos porque nadie más lejos que un hombre de paz que otegi porque por mucho que él lo diga por mucho que el entorno abertzale lo repita una y otra vez por mucho que algunos

no es un preso político no lo es o es que para usted sí lo es señor lehendakari para el gobierno vasco para usted

porque esa es la primera cuestión que debiera aclarar porque eso influye y mucho en la actuación de su gobierno al respecto porque el gobierno vasco ha dicho que aboga por una incorporación normalizada de otegi a la vida política

que se obvie la sentencia de inhabilitación porque no hay que olvidar

que no fue condenado por motivos políticos no fue condenado por hacer política fue condenado

legalización que fue ratificada por el tribunal europeo de derechos humanos y que eran parte de eta lo reconocieron los propios miembros de batasuna para liberarse de la prisión

tiene tras de sí un pasado terrorista que algunos quieren obviar ese pasado terrorista al que etb en su página web lo llama estar al otro lado de la trinchera

señor lehendakari formó parte de eta durante dieciséis años

el mismo día que salió de prisión ese uno de marzo unos años antes el señor abaitua había sido liberado pero con una gran diferencia

nunca fue el mismo sin embargo otegi salió de la cárcel

y además diciendo que había quienes decían decíamos estar acosados esa información etb también esa ironía etb también yo cuando le formulaba la pregunta ponía de manifiesto que el gobierno vasco tenía que estar vigilante para que la salida de la cárcel no se convirtiera en un enaltecimiento en una especie de homenaje y la verdad es que

histórico se tratara se hicieron especiales en en jake

minutos de la noticia eso sí obviando en todo momento por los motivos por los que había estado en la cárcel por ello le pregunto le parece adecuado este tratamiento señor lehendakari cree que la televisión vasca debe tratar la noticia de la salida de otegi como si la de un héroe se tratara

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora llanos ha empezado usted con una serie de opiniones y además

cuando yo no me he manifestado sobre esta cuestión en todo caso lo que usted me formulaba en la pregunta por escrito era con qué criterios va a actuar el gobierno vasco para que la salida de la cárcel de un condenado por terrorismo no se convierta en un acto de enaltecimiento del terrorismo de eta y esto es lo que también en su última pregunta

cuestiones y yo simplemente le digo que el gobierno vasco va a actuar con criterios de legalidad

señora llanos mire la delegación del gobierno español en euskadi puso en conocimiento de la fiscalía de la audiencia nacional la convocatoria de los actos organizados alegando que podrían constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y fue la fiscalía y el juez eloy velasco quienes rechazaron la posibilidad de prohibir los actos

el derecho fundamental de reunión y de manifestación le recuerdo también señora llanos que el primer acto

ante la cárcel y la guardia civil sin ningún problema

que usted plantea de lo que pueda ser el acto en el velódromo de anoeta en democracia un acto organizado por un partido forma parte del ejercicio de los derechos de expresión y el de participación política y este es el criterio de legalidad y además aplicamos el criterio del sentido común

a que ustedes valoraran si quieren seguir haciendo de altavoz de los actos que organizan otros partidos políticos ha hecho referencia a e i te be y e i te be ha tomado sus decisiones profesionales en función del interés informativo de la noticia del interés informativo de la noticia la proporcionalidad es opinable

la proporcionalidad ahora bien está claro que no solamente en e i te be hemos visto las mismas imágenes

las mismas palabras en todos los medios de comunicación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna llanos andrea zurea da hitza

si usted considera que es un preso político se lo pregunto al lehendakari del gobierno vasco porque eso influye mucho en cuál es la actuación después del gobierno vasco y cuál es la actuación de e i te be

además del tiempo falseó en ningún momento dijo porqué había sido condenado en ningún momento dijo que por intentar formar un partido abertzale cuando eso es radicalmente falso cuál es el tratamiento que se le da si habrá conexiones especiales el próximo sábado ya digo como si la llegada del hombre a la luna fuese yo creo que es

y la etb depende del gobierno vasco y no es igual

de cómo se trate y como le digo además de obviar pertenecer a eta se le llama estar

señora llanos ya me he referido en anteriores ocasiones sobre el concepto de presos políticos

las circunstancias que pueden afectar también a determinadas reivindicaciones

hace usted una crítica que etb falseó y me imputa a mí el falseo supuesto de etb por no decir cuál fue la condena

yo creo haber escuchado también al señor otegi en las imágenes reproducidas por etb por etb

a los acosados mire e i te be responde de su programación y usted cuenta con foros en la comisión de control de este parlamento y en el consejo de administración para solicitar todas las explicaciones que requiera usted ha justificado aquí su pregunta en un supuesto en una suposición y le leo

parece que se está organizando un homenaje en el velódromo de anoeta y parece que y que desde la televisión pública vasca también se va a hacer

bien sobre esto ha construido su pregunta señora llanos mire yo le contesto con que la posición de nuestro gobierno responde a un compromiso auténtico y real con los derechos humanos

gracias presidenta el impulso

general de la comunidad autónoma vasca se está realizando gracias al empeño de mi grupo parlamentario los socialistas vascos los datos cantan mucho y voy a decir por qué el veintinueve

dos representantes de comisiones obreras en la administración general del gobierno vasco para exponer la falta de impulso del inicio de la elaboración

del dos mil trece fruto de esa iniciativa y de una pregunta realizada también por mi grupo se incluyó esa cuestión en la mesa sectorial de negociación

que permita elaborar ese diagnóstico de situación con el cual poder confeccionar posteriormente el plan de igualdad se incluyó ese punto en el orden del día

de ese mismo año se aprobó una enmienda transaccional ante una proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario la cual fue firmada por mi

y apoyada por los grupos eh bildu y upyd en el punto primero de la enmienda transaccional que presentamos nosotros

con las secciones sindicales del plan de igualdad de la administración general de la comunidad autónoma vasca

finalizado el mismo a la mayor brevedad posible el parlamento vasco insta al gobierno vasco para que tenga en cuenta todo esto y luego para cumplir

presentaron ustedes con fecha cuatro de diciembre una propuesta de trabajo para la elaboración de ese primer plan de igualdad un día antes realizarse la comparecencia suya señor consejero en esa comisión y la directora de emakunde qué casualidad en aquella comparecencia

agradecía nuestra preocupación por que su elaboración era una obligación y estaba bien que nos preocupáramos de su impulso y arranque pero luego señor consejero

y hasta la fecha llevan la velocidad para su puesta en marcha

para su elaboración se establecían cuatro fases en una primera fase de comunicación de ese compromiso de elaboración del plan de igualdad una segunda fase de diagnóstico previo de situación sobre condiciones laborales del personal al servicio de la administración general desde la perspectiva de género y dentro de ellas

y cuatro de los sindicatos y luego dependiendo de la misma la constitución de un grupo de trabajo y la determinación de la información que ha de tener en cuenta la recogida de esa información análisis y por último la elaboración del diagnóstico previo de situación

al servicio de la administración general este diagnóstico debería ser validado por último por la comisión técnica para elaborar ese primer plan de igualdad

iniciar en una tercera fase la elaboración del borrador del plan de igualdad y en una cuarta fase la de negociación de ese plan de igualdad pues bien señorías quince meses más tarde

sin concluir además en la segunda fase de dicho proceso según el calendario aprobado en la mesa sectorial y aceptado por el consejero señor erkoreka el diagnóstico previo debería haberse concluido en el tercer trimestre del dos mil quince es decir

y el inicio de la elaboración del borrador del plan de igualdad tenía que haberse ya iniciado y desarrollado durante el cuarto trimestre del año pasado y durante el primer trimestre

y la última reunión de la comisión técnica se ha realizado hasta ahora el catorce de diciembre del año pasado

las pilas a iniciativa nuestra es decir nosotros incluimos en la interpelación el martes para el pleno

a los sindicatos el primer borrador de diagnóstico seis meses más tarde de lo previsto en su calendario inicial y a remolque y convocan la próxima reunión de la comisión técnica después de no haberse reunido nunca durante todo este año para

y presentan de forma unilateral y sin acordar en mesa sectorial un nuevo calendario remodelado esta vez unilateralmente por ustedes sin que pase por la mesa

y donde recoge que un calendario para realizar todo lo que no se ha realizado ahora

y que se inicie ya en mayo de dos mil dieciséis la negociación y junto con este calendario acompañan el primer borrador de diagnóstico

lo que no han hecho durante todo un año y en el primer calendario no tenían ustedes previsto

tenían previsto que esa elaboración se iba a ir realizando durante tres trimestres para pasar ya en el cuarto trimestre a la negociación del mismo

se pueda realizar bien lo que no se ha realizado en tantos meses y yo me pregunto qué habría pasado si no

que habría dormido el sueño de los justos eso no es serio señor erkoreka impulse de una vez y en serio la elaboración del primer plan de igualdad de la administración general de la comunidad autónoma vasca y déjese de retrasos y más retrasos su elaboración es una obligación y usted lo sabe marcado en el artículo cuarenta y cinco de la ley tres barra dos mil siete para la igualdad efectiva

donde se señala la obligación de elaborar ese plan de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores los cuales habrán de ser negociados también se recoge esta obligación en el artículo cuarenta de la ley cuatro barra dos mil quince de dieciocho de febrero y en la disposición adicional séptima del real decreto legislativo del treinta de octubre de dos mil quince

básico del empleado público y también en el artículo setenta y tres del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de las administraciones de la comunidad autónoma

de los laborales al servicio de la administración del estado es decir la obligación está clarísima y recogida en multitud de normas no hace falta que destaque la importancia de su elaboración y del cumplimiento de las normas anteriormente indicadas

se pone de manifiesto también en los diferentes planes de igualdad

entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma pues háganlo ya pero bien hecho

tiene un gran valor y por tanto habiendo transcurrido más de un año desde la aprobación de la proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario sin tener elaborado todavía el plan le

la siguiente interpelación cuáles son los motivos por los cuales no se ha cumplido el mandato parlamentario que insta a la elaboración de un plan de igualdad en la administración general

expresándole mi sorpresa no por la interpelación que presenta que por supuesto usted es libre

mejor desee sino por los concretos términos en los que la formula

unos días usted concluía la parte expositiva con una pregunta que decía literalmente

por los que no se ha cumplido el mandato parlamentario que insta a la elaboración de un plan de igualdad para la administración general de la comunidad autónoma vasca es una pregunta que hoy ha reproducido aquí

y le digo que me permita que exprese mi sorpresa por los términos de la formulación porque en primer lugar no se ha incumplido hasta la fecha ningún mandato parlamentario

efectivamente hablaba de una fecha del uno de diciembre para acelerar los trabajos pero hablaba de elaborar el plan

en el plazo más breve posible plazo más breve posible que yo intenté

comparecencia a la que usted ha hecho referencia intenté concretar de qué manera se podía materializar después le explicaré lo que hemos hecho a partir de entonces por tanto

no solamente no se ha incumplido ningún mandato parlamentario desde luego no el del veintisiete de noviembre del año dos mil catorce ese mandato si usted

no está incumplido pero es que además hay que poner en valor otro dato y es que

cumplimiento a mandatos legislativos que usted ha citado que datan del año dos mil siete y compromisos laborales derivados de

que datan del dos mil diez desde el dos mil siete ha habido diferentes gobiernos ninguno de los cuales ha prestado la más mínima atención a este asunto ninguno ni un solo minuto

inicia los pasos encaminados a la puesta en ejecución de esos mandatos legislativos recogidos efectivamente en normas jurídico positivas vigentes desde el año dos mil siete y de compromisos

vamos a poner en valor lo que hay yo creo que pensaba que esto había quedado bastante claro en aquella comparecencia

que se desarrolló creo recordar en un clima de sintonía de buena disposición para colaborar por parte de todos

con el desarrollo de los trabajos encaminados a la elaboración del plan por tanto incumplimiento no hay y sí hay un compromiso efectivo y le voy a reconocer efectivamente el interés que usted desde el principio de la legislatura está mostrando en relación con este asunto se lo reconozco sin ambages

que se está desarrollando que no lo estoy desarrollando yo personalmente sino que está desarrollándolo un grupo un colectivo de empleados públicos y de representantes del

meritorio digno de aplauso y de reconocimiento por parte de todos en relación con

que fue solicitada por usted yo hablé presenté un cronograma de actividades no solamente expuse lo que el gobierno había hecho hasta aquel momento sino que presente un

señalando lo que en cada momento iba a hacer para culminar los trabajos en la aprobación de un plan de igualdad para la igualdad

bueno en aquel momento hablaba de cuatro fases la primera fase iba a ser

de la viceconsejería de función pública en relación con la elaboración de este plan para la igualdad un compromiso que forma parte digamos de los protocolos establecidos en relación a la aprobación de estos planes de igualdad y era imprescindible hacerlo un compromiso que se iba a desarrollar durante el primer trimestre del año dos mil quince

trimestres del año dos mil quince que tenía por objeto elaborar el

quiero llamar la atención sobre la importancia que no yo los técnicos especialistas en la materia atribuyen a la elaboración de un buen diagnóstico porque un plan de igualdad que contempla normalmente medidas correctoras necesita de un buen diagnóstico bien fundamentado

contrastadas valoradas bien analizadas y fundamentadas con datos creíbles que reflejen claramente cuál es la situación y cuáles son las desigualdades y

una tercera fase que consistía en la elaboración propiamente del plan que iba a desarrollarse también durante tres trimestres

para la negociación del plan elaborado previamente con las organizaciones sindicales

todavía faltan unos meses para que podamos empezar

qué se ha hecho desde entonces bien desde entonces se han hecho

mucho y bien cuando digo mucho quiero decir con dedicación y con intensidad y cuando digo bien quiero decir que con rigor y con seriedad y en estos momentos además quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo realizado y felicitarles y agradecerles

tanto en la comisión técnica como en los grupos de trabajo vienen trabajando durante estos últimos meses para dotar al gobierno vasco

y pueda servir de referencia para otras organizaciones administrativas muchas de las cuales todavía están pendientes de la puesta en marcha de las previsiones

la segunda la del diagnóstico previo experimentó modificaciones

no a propuesta de este consejero a propuesta de la propia comisión técnica paritaria

y de la dirección de relaciones laborales y otras cuatro de la representación del personal cuatro sindicatos por tanto y cuatro técnicos de la administración pública

de una persona técnica también de estas direcciones bien

iba a iniciarse en la tercera fase pide con la fuerza de la representación sindical monitorizar el proceso desde el principio y exige constituirse

pide por tanto que se alteren los trabajos el orden de los trabajos el cronograma que yo he expuesto de manera que el trabajo pueda ser auspiciado dirigido

por tanto se adelanta la constitución de la comisión técnica al día seis de febrero del año dos mil quince y es la comisión técnica de composición paritaria con representación sindical la que monitoriza impulsa y diseña el trabajo la comisión técnica

y trabajan lógicamente a petición de la propia comisión elaborando informes aportando datos trabajos estadísticos aportación y asesoría técnica especializada procedente de técnicos de igualdad los grupos de trabajo

se reúnen digamos informalmente porque tienen composiciones muy diferentes y no hay actas que recojan sus reuniones pero la comisión técnica sí el seis de febrero el tres de marzo el veintisiete de marzo el veintidós de junio y el dieciséis de noviembre por lo que se refiere al año dos mil quince varias reuniones por tanto en las que va reformulando los trabajos y la planificación previamente establecida como usted comprenderá yo no tengo ninguna intención en interferir en esos trabajos y en alterar el orden de

insisto integrada por personal especializado y por la representación del personal la comisión técnica propone incorporar dos elementos al proceso de elaboración que no estaban previstos en el cronograma inicial primero

curso específico diseñado ad hoc para

que está elaborando planes de igualdad cursos que diseña emakunde que configura emakunde y se encomienda a una empresa especializada y homologada

y una encuesta de personal una encuesta de personal que se hace también durante dos meses a petición de la propia comisión técnica y que arroja un resultado excelente para incorporar al diagnóstico en este momento el diagnóstico está ya elaborado lo tengo aquí

socialización del diagnóstico para remitírselo a todas las instancias que puedan hacer alegaciones el compromiso para culminar los trabajos incluso con antelación a lo realmente previsto y a lo por mí comprometido ante la comisión es total

por tanto se está trabajando bien con rigor y felicito a quienes lo están haciendo posible muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna sánchez andrea zurea da hitza

vamos a ver señor erkoreka que se han iniciado los trabajos

que se encuentran en este momento en la segunda fase de las cuatro previstas pero también he puesto de manifiesto que calendario que se elaboró y que no había sido corregido en absoluto

hasta el miércoles de esta semana le vuelvo a repetir

la fase del diagnóstico se tenía que haber terminado para el cuarto trimestre del dos mil quince y ya tendríamos que estar avanzando en la elaboración

en la elaboración del plan de igualdad y se tendría que haber ido desarrollando durante este primer trimestre y finalizando tal cual estaba establecido en ese calendario

en el segundo trimestre de este año sin embargo estamos ahora en marzo donde teníamos que estar

acaban de recibir los sindicatos el borrador de diagnóstico

que durante el inicio de este año se había producido una paralización de este tema de hecho usted ha puesto de manifiesto

desde el año pasado no había reuniones de la comisión técnica y eso es así y gracias probablemente a esta iniciativa se ha vuelto a dar el impulso otra vez es decir se ha vuelto a correr esta semana se mete el martes la interpelación para

para correr y llegar al pleno con un calendario nuevo y poder decir no es que ya tengo aquí he remodelado las fechas y ya lo vamos a terminar

porque yo doy también importancia a la elaboración correcta del plan es que

en dos meses en este nuevo calendario se ve que ha metido desde el once de febrero está metido hasta mayo del dos mil dieciséis hay que elaborar

el plan de igualdad cuando en el primer calendario toda su elaboración tenía previsto nueve meses

para tener la elaboración antes de iniciar la cuarta fase que es la fase de negociación

eso es una realidad ustedes lo han presentado el miércoles a las tres de la tarde yo tengo constancia de ello por tanto yo creo que dado la importancia que tiene el tema lo que yo le pido es que se pongan a trabajar se realice correctamente el plan de igualdad yatienen el borrador todavía con eso

de aprobación de ese borrador en la comisión técnica para empezar a iniciar a elaborar el plan de igualdad entonces háganlo bien y se elabore correctamente porque mucha importancia ese plan de igualdad además va a ser el primero de la administración general pero

no lo vuelvan a dejar dormir ahí y si dentro de unos meses porque yo he tardado un año después de aquella comparecencia yo

el tema al pleno de la cámara pero claro cuando a mí me dicen

tres meses y desde el año pasado está durmiendo el sueño de los justos otra vez el tema

que por favor agilice el tema y lo hagan correctamente que es lo que se les pidió

cuando se aprobó la proposición de ley también por parte

en la comisión de derechos humanos entonces por tanto yo le pido que lo hagan bien

y no se salten la fase de negociación final a ver si por las prisas ahora lo traigo lo elaboro deprisa y corriendo y para que esté en dos días ni negocio porque le llevo

y me salto la última fase para venir aquí esa fase última

se tiene que elaborar y tiene que ser negociado ese calendario nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea erkoreka jauna erantzuteko zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora sánchez en mi primera intervención me he esforzado denodadamente por intentar transmitirle la idea

las modificaciones operadas hasta la fecha en el calendario de trabajo arrancan todas de propuestas formuladas por la comisión técnica de igualdad

y por representantes de los trabajadores una representación sindical que está puntualmente al tanto del trabajo que se desarrolla trabajo que materialmente es

pero que la comisión técnica supervisa impulsa y monitoriza

la que entre otras cosas plantea enriquecer el proceso de formulación del diagnóstico llevando a cabo actuaciones que no estaban previstas en el programa inicial entre otras cosas un curso al que antes he hecho referencia que era imprescindible que era bueno

las personas que están formando parte de la comisión técnica y la representación sindical segundo

decide que sería positivo plantear una encuesta al personal de la administración general y plantea una encuesta que dura dos meses y a la que responden trescientos treinta personas de la administración con aportaciones importantísimas que se incorporan al diagnóstico claro usted me dice acelere apriete desde luego yo no tengo ninguna intención de interferir en las propuestas de reformulación que plantee la comisión técnica con representación sindical entre otras

retrasar los trabajos un mes dos meses tres meses para incorporar elementos nuevos al procedimiento

desde luego no seré yo quien lo impida no porque son ellos los que han hecho estas propuestas son ellos los que han formulado estas propuestas si usted me dice que era bueno decirles que no

y comuníqueselo a sus interlocutores de la representación sindical

o por su equipo de designación política en absoluto a mí me ha parecido que era bueno han puesto mucho énfasis ellos los especialistas en la importancia de la elaboración de un diagnóstico bien fundamentado y acertado

que la formación de las personas que están trabajando en la elaboración del plan para la igualdad sea la mejor posible y por eso han querido que se incorporen también los datos procedentes de las encuestas de esa encuesta a la que antes he hecho referencia esto arranca de la propia comisión técnica que es la que ha articulado en el tiempo la materialización del procedimiento

y son los grupos de trabajo que prestan asesoría asistencia e información y datos de todo tipo para alimentar la elaboración del diagnóstico son ellos

bien hecho primorosamente elaborado como parece que es este que tienen aquí

que no se improvisa esto no se improvisa de la noche a la mañana para responder a una interpelación que ha registrado hoy usted no esto no se improvisa esto está planificado claro es que los empleados públicos tienen vacaciones en navidad y a partir de navidad

a una persona que conoce el funcionamiento de la administración pública y el once de febrero

que para la presentación de un diagnóstico que viene trabajándose entre otros por técnicos que han recibido cursos de formación específicos en diciembre a este respecto pues no es una fecha excesivamente dilatada en el tiempo yo entiendo que usted tiene que inflar las notas críticas

una interpelación pero reconozca que el trabajo se está llevando a cabo con rigor con respaldo con seriedad con asistencia técnica y que el tiempo que ellos ellos los integrantes de la comisión técnica y de los grupos de trabajo creen que sería suficiente para poder presentar el plan desde luego no excede no supera

de diciembre del año dos mil catorce no supera estaremos en tiempo estaremos en plazo y con un trabajo rigurosamente elaborado con el respaldo de todas las partes que es yo creo en este caso en este tema era el objetivo común y compartido pensaba que lo era por parte de todo el mundo esto está así el compromiso es efectivo el diagnóstico está ya elaborado el borrador de diagnóstico y se inicia a tramitar ya a partir de aquí dicen los especialistas que la elaboración del plan

muchas gracias señora presidenta señora consejera le hacemos

de lo que ocurre con la acb que en realidad ya no es la acb es prácticamente todo el sector siderúrgico vasco es la acb son tubos es nervacero

qué era lo que el gobierno vasco además de pedir a otros que hagan qué estaba haciendo el gobierno vasco entre la pregunta y hoy

el gobierno vasco estaba buscando un inversor en el deia digo yo que el deia sabrá sabrá bastantes cosas y al hilo de esa noticia pues pues uno empieza a mirar un poco atrás qué es lo que ha pasado

su participación la bbk vendió su participación y al parecer digo al parecer porque nosotros evidentemente no tenemos esa documentación

cinco años y esos cinco años casualmente terminan dentro de un mes

si vendía o cerraba y digo todo esto al parecer porque todo esto se publicó

el gobierno vasco tenía un derecho de tanteo digo al parecer porque no lo sé pero al hilo de la noticia que sale y de estas actuaciones que supuestamente el gobierno está haciendo

si están haciendo esto de verdad cuál es el planteamiento de verdad que está haciendo el gobierno vasco porque ayer en el debate que tuvimos sobre una proposición no de ley

dije esto y otro portavoz de otro grupo dijo que hombre cómo es que se publica en un medio de comunicación algo que habíamos que se había acordado que iba a ser discreto discreto bueno yo no sé la discreción exactamente dónde va yo sé que hoy por ejemplo arcelor se ha revalorizado un sesenta por ciento en bolsa es decir no es una empresa que va tan mal ni una multinacional que tiene tantas pérdidas

aparte de la genérica que le hacía es si el gobierno vasco

se está planteando la salida del grupo mittal y lo que se está planteando

para luego buscar un inversor o al revés hacer de intermediario como viene en la noticia

que le responda directamente a lo que me preguntaba por escrito y después entramos en lo siguiente si le parece

sino desde hace bastante tiempo intensamente con todo el sector siderúrgico en diferentes ámbitos y se los voy a decir en primer lugar la formación continua de sus trabajadores

el desarrollo de nuevas inversiones sobre todo para mejorar la eficiencia energética de las diferentes plantas que tenemos en euskadi la financiación

procesos que garantizan la calidad y desde luego me gustaría además reconocer esfuerzos salariales por parte de los trabajadores pero esto no ha sido suficiente porque nos hemos encontrado por una parte

se ha venido a realizar una política energética que en lugar de primar

entre otras de la industria siderúrgica ha venido a trabajar solamente con la reducción

eso ha venido a de alguna forma conseguir que la tarifa energética grandes consumidores como la siderurgia sea muchísimo más elevada que la de cualquier otro país

pero nosotros hemos hecho propuestas para mejorarla no han sido atendidas nunca ni desde septiembre de dos mil trece que hicimos la primera ni hasta este martes pasado que hemos hecho la última a esto ha venido a añadirse además el dumping chino que provoca que en este momento entre tanto acero en europa

en todos los países conjuntamente a precios por debajo de coste y a pesar de todas las mejoras que se han introducido insisto con la ayuda del gobierno pero también con todos los trabajadores ha

donde hay un ere en estos momentos temporal pero un ere
de otras empresas pero el tema energético en concreto por el que usted preguntaba la responsabilidad está donde está eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea damborenea jauna zurea da hitza

señora consejera el tema energético está más barato más barato por entre otras cosas

que se hizo en madrid con ustedes en la nueva ley que regula la energía está más barato

el gobierno vasco vendió su participación en la acb más barato mucho más barato por lo tanto no me venga con la excusa

del tema de la electricidad y yo le he vuelto a preguntar y usted me dice el gobierno vasco ha hecho muchas cosas yo no le voy a decir que no ha hecho nada está claro y es evidente para todo el mundo es que han sido insuficientes habrán hecho muchas cosas

por lo menos para que la competitividad de nuestras empresas sea mejor o viable y le voy a decir por qué el tema de la energía es falso

por lo tanto ese no es el problema y la pregunta que le he hecho al principio y se la vuelvo a hacer ahora es a ver si es verdad que transcurrido el plazo
arcelor puede cerrar la planta tal y como ustedes acordaron eskerrik asko damborenea jauna amaitu da denbora

eskerrik asko presidente andrea si vamos a la venta señor damborenea fue hace cinco años y bueno

ahora bien sí es cierto que caduca el uno de abril de dos mil dieciséis sin embargo las conversaciones mantenidas con acb

permiten decir que eso no va a ser una realidad es decir ni se va a vender la planta no hay voluntad de venta ni se va a cerrar

siempre y cuando haya voluntad por parte de arcelormittal de vender que en este momento no existe por tanto

al que usted hacía referencia que aparece en deia pero no estamos en ese escenario en este momento existe pero no estamos en ese escenario

cuya rebaja se consiguió estábamos en una situación por la cual los consumidores que estaban conectados a treinta kilovoltios

estaban pagando cien millónes de euros más en el conjunto de euskadi que los vecinos de cantabria de la rioja o demás hemos conseguido rebajar

y acb no tiene nada que ver en ese sentido acb está ligado a una factura en la cual los extracostes entre otras cosas del carbón

y se les está cobrando unas tarifas diferentes no está afectada por los peajes está afectada por la interrumpibilidad que por cierto su gobierno tampoco quiere atender

pues sí evidentemente me parece fundamental que se realice ese trabajo de contacto y seguimiento permanente porque estamos hablando de una empresa que tiene un peso sustancial en la economía vasca estamos hablando antes decía que la primera empresa en valor bursátil

en bolsa tanto como cie automotive vidrala portland valderrivas tubacex

pasando una empresa puntera una de las auténticas referentes

tecnológico importante relacionado con las energías renovables que nos parece que es estratégico

el que se redoble ese esfuerzo por mantener aquí el conjunto de las estructuras de dirección y la mayor red de productores de producción y de suministradores posible

entre las dos empresas y digamos que en medios de prensa económica internacional especializada se habla abiertamente de adquisición podría leer ejemplos del financial times está en conversaciones para la adquisición de gamesa siemens

gamesa es una de las últimas adquisiciones creíbles

cuidado con eso de fusión porque es difícil fusionarse con siemens y por tanto

y en este país conocemos y tenemos casos sangrantes como euskaltel como kutxabank con privatización parcial y reducción de peso

tenemos problemas de diferentes índoles un problema de falta de diversificación productiva tenemos un problema de atraso tecnológico

de los parámetros europeos no ya de los avanzados sino de los parámetros medios tenemos un problema también de deslocalización productiva

de centros de producción me alegra en cierta medida que usted manifieste esa preocupación y nosotros seguiremos muy de cerca ese trabajo que también queremos que concluya con el mantenimiento de

casanova jauna tal como le decía en estos momentos los datos de los que nosotros disponemos hablan de una fusión de la

con gamesa y es una fusión insisto entre el cuarto y el quinto productor

con esta fusión se llegaría a tener una empresa que sería la primera productora en energía eólica y de alguna forma complementaría en capacidades puesto que siemens tiene capacidades en producción de generación

y en este momento gamesa sería un fabricante

de generadores onshore por tanto diferentes especialidades y además diferentes mercados

en países vamos a decir de un nivel económico algo diferente vamos a decir emergente o como lo queramos considerar diferentes pero también

tienen una capacidad muy potente por lo tanto mercados y tecnologías que realmente son complementarias

con gamesa en el centro de fabricación avanzada

tratando de que esos proveedores trabajaran de forma conjunta y previeran de soluciones a gamesa y a en sus nuevas necesidades

no le quepa a usted la menor duda y desde luego nos alegra que ustedes también estén preocupados por este tema lo vamos a seguir haciendo con siemens y gamesa si se fusionan y lo vamos a seguir haciendo si no se produce la fusión con siemens por una parte y con gamesa por otra porque creemos

no podemos estar fuera de esos ámbitos tecnológicos en los que en este momento se están produciendo las mayores ventajas competitivas para nuestros proveedores y nuestras empresas luego es un trabajo que ya estamos haciendo pero que vamos a continuar

doce de noviembre se aprobó un acuerdo en esta cámara con una amplia mayoría

a presentar a la creación a la elaboración de un plan especial para impulsar el empleo en las zonas desfavorecidas de álava

entendemos que álava ha sido discriminada respecto a bizkaia y gipuzkoa teniendo en cuenta que

que contempla ayudas subvenciones un programa de subvenciones a empresas que realicen inversión productiva generadora de empleo en zonas de gipuzkoa y de bizkaia concretamente en las zonas de la margen izquierda del río nervión

sucesivas se ha aprobado una cantidad de ocho millónes cada una de ellas es decir estamos hablando de dieciséis millónes de euros cuando álava se ha quedado fuera de esos programas de ayudas estos programas de ayudas hay que enmarcarlos en un mapa de ayudas

en mayo de dos mil catorce y que permite la concesión de incentivos regionales para la promoción de la inversión empresarial por lo tanto estamos hablando de un programa de ayudas muy importante y un programa ya de ayudas dirigido especialmente a empresas radicadas como digo en territorios

que he hecho referencia las empresas de álava se han quedado fuera se ha excluido por lo tanto a municipios alaveses que además tienen

consideramos desde el grupo popular como ya lo pusimos de manifiesto en el debate de la proposición no de ley en el pleno del doce de noviembre

decíamos que el municipio alavés y las empresas radicadas en el territorio histórico de álava habían sido claramente discriminadas respecto a las empresas radicadas en los territorios vecinos de ahí que dada la motivación fue esa la discriminación

esta iniciativa para que el gobierno vasco creara este plan esta parlamentaria en la comparecencia de los presupuestos posteriormente al debate de esta iniciativa porque como digo se debatió en noviembre

presupuestos ya preguntamos al propio consejero

alguna previsión presupuestaria en relación a la elaboración de un plan especial de empleo para álava y el consejero nos dijo que no había tal previsión

una enmienda específica que se traslada en una subvención hacia la diputación de álava una preferencia que es una subvención a la diputación foral de álava

el empleo tengo que decir que el grupo popular y viendo la cantidad del programa indartu que eran ocho millónes de euros el año pasado viendo que este año son ocho millónes de euros

subsanar ese desequilibrio con el territorio de álava en estos programas de empleo consignar una partida de tres millónes de euros que quiero decir que fue rechazada y la que fueincorporada

es absolutamente insuficiente viendo los dieciséis millónes de euros en total

creemos que sería de justicia que a álava le pudieran corresponder tres millónes de euros nosotros recientemente hemos hecho

al señor consejero sobre esta cuestión a ver cómo se había cumplido

ese acuerdo de la elaboración de un plan especial de empleo para álava y la contestación ha sido la remisión

euros que de lanbide se materializará en una asignación económica a la diputación

de álava desde luego nosotros la consideramos absolutamente insuficiente y desde luego entendemos que por parte de este gobierno y dada también la respuesta que se nos ha dado de simplemente limitarse a esa partida de quinientos mil euros cuando ya digo nuestra enmienda era de tres millónes

entendemos que no hay una intención por parte de este

que hay con el territorio histórico de álava y que una vez más

en un asunto muy importante cuando estamos en un momento de recuperación económica de consolidación

la competitividad de nuestras empresas de nuevo llegan las migajas a álava existe por lo tanto una agravio comparativo que no está siendo

pedimos en ese sentido explicaciones al consejero y por eso formulamos esta interpelación porque entendemos desde el grupo popular que volvemos a asistir a ese olvido hacia álava en una materia absolutamente sensible

de empleo y cuando además por la especial configuración geográfico del territorio alavés y también por la especial característica de ciertas zonas y las cifras del desempleo que tienen desde luego merecen una atención especial y merecen para compensar el que haya sido excluida álava de ese programa

de un plan específico de empleo para álava para las zonas desfavorecidas por eso le preguntamos al consejero si aparte de la subvención que ha sido mencionada de los quinientos mil euros incorporada a la aprobación de los presupuestos tiene pensado este gobierno

y así subsanar de una vez por todas la discriminación en materia de empleo que existe en el territorio histórico de álava besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

moduan nagoela esan dezaket pero sí le tengo que decir

al que usted hace referencia no es de nuestro departamento sino del departamento

que por lo tanto entiendo que está usted tergiversando y comparando datos que no son en absoluto comparables

la interpelación en el sentido en que usted la ha hecho debería ir dirigida a otro departamento y no al nuestro no tengo por lo tanto más que posibilidad de

de nuestro departamento en relación con las acciones que hacemos en álava son las convocatorias de ayudas locales precisamente las que desarrollan los planes de empleo

permítame que le explique cómo se articulan estas ayudas lanbide a través de estas ayudas trata de contribuir

lanbide a través de estas ayudas favorece la configuración de mercados de trabajo que contribuyan de la manera más eficiente posible a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras

así como favorece la cohesión social y territorial a través de la gestión de las políticas de empleo y uno de los principios a los que lanbide tiene que adecuar su actuación

a la realidad local tal y como se recoge expresamente en el artículo dos de la ley tres barra dos mil once

se atribuye a este organismo autónomo una serie de funciones entre las que se encuentra entre otras la propuesta de ordenación y planificación general sectorial territorial de las políticas públicas en materia de empleo y en un plano más concreto y directamente relacionado con la dimensión local de las políticas de empleo

promoviendo en colaboración con las entidades locales el desarrollo de pactos locales por el empleo el ámbito local es el idóneo para detectar nuevas posibilidades productivas y por lo tanto resulta imprescindible que las políticas de empleo en su diseño y modelo de gestión tengan en cuenta esta dimensión local

de manera que impulsen actuaciones que contribuyan a aprovechar ese potencial y favorecer y apoyar iniciativas de generación de empleo y de actividad empresarial en este ámbito tal y como se encuentra previsto en la normativa básica

desde esta perspectiva y como primer paso para el desarrollo de la dimensión local de la política de empleo era preciso conocer la realidad del territorio

de álava detectar las posibles medidas de fomento de empleo a aplicar en cada una de ellas potenciando el papel de las entidades locales como motoras de la creación de empleo

en profundidad realizado podemos extraer el dato de las zonas de araba con mayores tasas de desempleo que son las siguientes oyón veinticinco por ciento han descendido algo porque estamos hablando

oyón veinticinco por ciento llodio diecinueve coma uno por ciento

de este modo y al amparo de la orden de nueve de mayo de dos mil doce

estudios en profundidad de cada comarca construidos compartidos y elaborados con el mayor grado de consenso por las instituciones y entidades de ámbito local agentes sociales empresas y otras entidades que colaboran con el desarrollo económico y social de las comarcas de cada comarca o de algunos de los municipios que los forman

se derivaron proyectos concretos que perseguían el impulso del empleo y el desarrollo local superando los desequilibrios generados por los cambios en el mercado de trabajo

desarrollan tres líneas de actuación en nuestro departamento repito en nuestro departamento

que su interpelación ha ido con otras cifras y de otro departamento

directamente por las entidades locales incluidas las entidades dependientes de las mismas

de personas con dificultades especiales dos

que la entidad local capta en la práctica totalidad de los casos a través de convocatorias especiales de ayuda y tres y ahí termino

otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo dirigidas a aquellas comarcas y municipios especialmente afectados por el desempleo

se recogen tanto actuaciones de los tipos uno y dos antes descritos que no han podido ser cubiertos por la dotación de fondos asignadas así como otros tipos de actuaciones novedosas

y que conllevan la creación de empleo además de las acciones tipo uno y dos descritas se subvencionan también en estas de tipo tres propuestas o proyectos que recogen actuaciones

queda claro pues que no solo vamos a cumplir con lo establecido vía enmienda parlamentaria si no que ya existían medidas propias al efecto por entonces eskerrik asko

gracias señora presidenta bueno señor consejero los hechos son los que son los hechos son dieciséis millónes de euros para bizkaia y gipuzkoa

para álava pero además introducidos a través de una enmienda de un grupo

tres millónes como digo con un crédito de compromiso que ustedes desecharon y rechazaron e introdujeron

para el territorio histórico de álava desde luego entendemos que con esa

desde luego no se subsana la discriminación existente usted me habla del tema competencial hombre yo entiendo el gobierno y cuando

y más cuando estamos hablando de políticas de empleo y

y más cuando está lanbide con competencias propias

de empleo que ustedes además han reclamado insistentemente y que también vinieron con cierto retraso por algún que otro obstáculo

pues no las desarrollan debidamente y aquí ustedes en el departamento que usted dirige

para haber subsanado este desequilibrio evidente con el territorio histórico de álava y además no me diga la cuestión de los departamentos cuando precisamente la enmienda

en su propio departamento se ha introducido en lanbide y es una subvención

dice está haciendo alguna actuación al respecto

es que ustedes han vuelto a incumplir un mandato de este parlamento porque desde luego este grupo parece ser que ustedes sí este grupo no se puede dar por satisfecho con que a álava lleguen quinientos mil euros cuando a bizkaia y a gipuzkoa están llegando dieciocho millónes de euros

están llegando los restos y desde luego creemos que es una cantidad

paliar situaciones de desempleo en municipios que como usted mismo ha dicho tiene unas tasas de desempleo considerables como son oyón con un veinticinco por ciento de paro o llodio con un diecinueve coma uno por ciento pero es que luego

de otra serie de convocatorias de las convocatorias de los planes locales y comarcales de empleo cuando este grupo

iniciativas en lo que va de legislatura porque precisamente ha habido una nueva inacción de este gobierno en materia de empleo en el retraso no solo de sacar esas convocatorias dirigidas a los ayuntamientos y estamos hablando de importe de veinte millónes de euros en cada convocatoria sino

este año de momento no ha salido y también hemos presentado una iniciativa al respecto sino en la resolución de las convocatorias el año pasado también se tuvo que debatir en esta cámara que salió un acuerdo porque laresolución del año pasado no se había producido por lo tanto

cuando estamos viendo una inacción absoluta en las diferentes actuaciones que puede desempeñar el departamento que usted dirige

a uno de los problemas más importantes que tenemos en un momento de incipiente recuperación económica en un momento

de nuestras empresas y en un momento en el que precisamente hay que consolidar esos datos que tenemos de la recuperación económica nuevamente señor consejero

pues vemos que una materia tan sensible que debería de ser absolutamente prioritaria para este gobierno

vemos que nuevamente todas las actuaciones que tienen que ver con el empleo

preside y nuevamente vemos cómo ustedes han sido incapaces por ahora de subsanar ese desequilibrio y ese agravio comparativo que existe en el programa indartu

histórico de álava cuando ustedes tienen competencias y las pueden ejercer le pedimos más voluntad plantearemos una moción y ustedes ahí tendrán posibilidad

de la misma de subsanar y desde luego de poner el dinero que le corresponde a álava para desde luego ocupar el lugar que le corresponde respecto a bizkaia y gipuzkoa que está claro que ustedes no le dan el lugar

sigue usted comparando partidas diferentes presupuestos diferentes de

a este consejero y a este departamento y por lo tanto yo no le puedo responder en nombres seguramente con otras partidas la situación de álava es completamente diferente no me confunda usted

la partida a la que yo he hecho referencia de quinientos mil euros

trabajando en las zonas desfavorecidas de álava a través de los planes locales de empleo siempre que así lo considere tanto la diputación foral como las autoridades locales también le tengo que decir que el plan de empleo está en vigor de dos mil quince hasta el treinta y uno

estarán ciertamente a partir de esa fecha y digo reforzar porque planes específicos como le vengo señalando existen en concreto en la convocatoria todavía en vigor del año dos mil quince en el artículo tres se establece una distribución del crédito según la tipología de acciones a desarrollar y según el importe asignado a cada comarca en el caso de araba se han destinado dos coma cinco millónes de euros para las actuaciones de tipo uno y dos dos coma cinco millónes fomento de empleo y ayudas a la contratación y uno millón de euros

y vamos solo en lanbide no estamos comparándolo ya con los otros departamentos y así en las zonas desfavorecidas de álava para los planes locales de empleo en dos mil quince se han destinado cuatrocientos mil euros al valle de ayala más de cien mil euros a la llanada alavesa casi otros cien mil euros a la rioja alavesa cincuenta mil euros a los valles alaveses cincuenta mil a las estribaciones del gorbea

no ha habido retrasos señora merino y no los va a haber este año y no me diga usted que álava está siendo mal tratada otra cosa es que lo quiera usted utilizar

en álava siempre pueden ganar un par de votos más con este discurso pero no me lo diga por favor

y en gipuzkoa donde también deben tener ustedes afiliados eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamabigarren galdera

sí gracias señora presidenta bueno espero señor consejero soy señora garrido

pero le tengo que decir que espero que en esta pregunta vaya al grano también tiene que ver con lanbide y con

ayudas sociales y se demuestra otra vez las deficiencias de funcionamiento de lanbide

de empleo según además los datos dados por su propio departamento uno de cada dos expedientes de ayudas sociales gestionadas por lanbide que han sido revisados incumple algunos de los requisitos establecidos

para la garantía de ingresos y para la inclusión social para el cobro de estas prestaciones económicas estamos hablando de rgi y de prestación complementaria

respuesta se nos dice que solo han sido revisados el treinta por ciento de los expedientes

en la mitad de ellos se han detectado irregularidades por lo tanto le preguntamos el señor consejero a través de esta pregunta qué valoración

que se han revisado por parte de lanbide presenten irregularidades cuando todavía queda el setenta por ciento de los expedientes por revisar estamos hablando del año dos mil quince

errenta politikoa ateratzeko bada y esto es lo que creo que usted ha hecho el departamento en respuesta a varias preguntas

le proporcionó a usted como no podía ser de otro modo los datos que solicitó con detalle y precisión y sobre la base de estos datos le tengo que decir señora garrido que usted construye una interpretación interesada

usted sabe que la información solicitada por su grupo parlamentario y facilitada en la respuesta se refiere únicamente a la suspensiones producidas mediante revisiones de oficio en negrita que fueron cuarenta y cinco mil ochocientos treinta los últimos tres años sin embargo interesadamente nos traslada aquí que estas son el total de las revisiones no señora garrido la totalidad de las revisiones realizadas por lanbide en los últimos tres años

usted manifiesta que lanbide revisa únicamente el treinta por ciento del total de los expedientes

revisados prácticamente en su totalidad y además dos veces al año de media si usted lo que desea trasladar a la opinión pública

inténtelo de otra forma pero por favor con rigor usted

ahí nos dice que en la mitad de los expedientes existen irregularidades para trasladarnos la idea de que el fraude es generalizado

causas diferentes por la que se suspende o extingue la prestación

ustedes tienen los datos no los tergiversen únicamente le pido rigor y responsabilidad en una cuestión como esta

de subsistencia se lo merecen eskerrik asko

y aquí viene claramente las revisiones en cada uno de los años

también la correspondiente a cada una y el total de ellas súmela y verá qué porcentaje sale del total de los expedientes

que no falte a la verdad en una respuesta que está firmada por usted y que está firmada por lo tanto por el responsable máximo de este departamento

desde luego los datos corroboran claramente que la gestión de lanbide les está desbordando señor consejero y lanbide también en los datos que usted nos ha dado y repáselos y sume todas las extinciones las distintas extinciones por qué causa son son evidentes y dicen

de los expedientes de ayudas sociales que ha revisado en el dos mil quince y las revisiones según el total que yo le he dado señor consejero es el treinta por ciento

y mire el total de los expedientes que se han revisado cada año por lo tanto le queda un setenta por ciento en el año dos mil quince de los expedientes por revisar pero también en el año dos mil catorce se revisaron un veintiuno coma cinco por ciento y en el año anterior se revisaron menos un diecinueve coma siete

por lo tanto señor consejero más que echar balones fuera y decir que los demás no leemos bien los datos o que manipulamos los datos porque creo que los datos son evidentes y además los puede conocer cualquier persona que quiera a acceder

ustedes qué pregunta se hacen cuando ven que están siendo incapaces de dar solución a los problemas que tienen en la gestión de las ayudas

problemas estructurales problemas que les acompañan desde el inicio de su funcionamiento y que incluso van a más aún a pesar

señora garrido cuarenta y cinco mil ochocientos treinta revisiones de oficio total de revisiones

analizando su interpelación y su intervención mucho me temo que por un puñado de votos

ustedes vayan a repetir un bochornoso espectáculo de pretender desprestigiar nuestro sistema vasco de protección social y en especial en poner esfuerzo en poner en cuestión el esfuerzo que estamos llevando para que lanbide pueda alcanzar mayores cotas de legitimación protejamos

en esos momentos la sociedad vasca y sigue pasando debido al crecimiento

y se acordó que el gobierno vasco debía de elaborar un plan específico de refuerzo de recursos humanos y materiales de la inspección de trabajo

el veintiocho de noviembre del dos mil catorce el anterior consejero de empleo y políticas sociales don juan mari

por mi grupo parlamentario los socialistas vascos indicó cual era la plantilla actual de la inspección de trabajo y se comprometió en dicha sesión el consejero en elevarla en seis inspectores más pretensión que afirmó entonces que ya estaba trasladada a la dirección de función pública y

este compromiso se exigió expresamente también en el parlamento el diecinueve de febrero del dos mil quince y se volvió otra vez a reiterar el dieciséis de octubre del dos mil quince

de otros puestos de la rpt de la inspección de trabajo ahora vacantes por lo que en principio no iban a suponer un incremento presupuestario sobre la rpt actual pero

en la comunidad autónoma vasca creo que en la actualidad estas plazas cuentan en estos momentos con el visto bueno

a la modificación indicada luego tendrá que pasar por la oficina de control económico y el ok definitivo antes de poder pasar al consejo de gobierno su aprobación

un año desde que el consejero asumió el compromiso y seguimos sin tan siquiera haberse creado esas seis plazas adicionales en nuestra comunidad autónoma no hablemos ya de cuándo saldrá el concurso para cubrir las mismas por eso consejero señor toña le formulo la siguiente pregunta tiene previsto cubrir y crear su departamento las plazas de inspectores

a las que se comprometió antes de mayo de este año

el refuerzo de los medios humanos de la inspección de trabajo del país vasco mediante la creación de seis nuevas plazas de inspector de trabajo y seguridad social ya lo sabe usted está en marcha

es voluntad de este departamento dotar de esos medios a la inspección de trabajo para que cumpla su función como garante de la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas

y los nuevos inspectores de trabajo y seguridad social nos permitirán reforzar la tarea que venimos realizando desde que adquirimos la competencia de la materia

consejero sé que se ha iniciado el proceso pero la cuestión es que ya llevamos un año con ese proceso sé que se van a crear

el resultado de la distribución va a ser diferente aunque es lógico puede ser lógico hay que buscar la mejor forma de cubrir las necesidades existentes y va a salir mejor con más plazas la inspección de

pero la situación de precariedad laboral que vivimos hoy es mucho mayor que la que existía hace cuatro años no es una opinión es una evidencia estadística se ha ahondado en la brecha salarial entre hombres y mujeres y se ha incrementado en un dos por ciento hasta alcanzar ahora la tasa anual del veinticuatro por ciento según datos del ine cerca de dos millónes de trabajadores

interprofesional o menos eso ha generado que se hayan incrementado más las desigualdades

tan importante que se creen el mayor número de plazas de inspectores de trabajo porque cuantos más efectivos más actuaciones se realizarán creen esas plazas de una vez

para que se saque el concurso para la cobertura de esas plazas y todos sabemos y somos conscientes que eso se va a retrasar este año

donde nos encontramos en la fase de formar un nuevo gobierno

la promesa que hicieron en noviembre de dos mil catorce dos años después de haberla prometido ejerzan sus competencias ya y tomen medidas efectivas
para combatir la pobreza y la desigualdad actualmente existente nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea toña jauna zurea da hitza

como he dicho antes señora sánchez es necesario el doble procedimiento que usted conoce primero activar el procedimiento administrativo de creación de las nuevas plazas proceso que el departamento de empleo y políticas sociales que dirijo inició en el segundo

gobernu kontseilutik pasatzea por otro lado una vez aprobado por el consejo de gobierno la ampliación de plazas en la relación de puestos de trabajo y realizadas las publicaciones oportunas es necesario realizar un procedimiento de concurso a nivel estatal

de dichas plazas por sus titulares el proceso de generación del concurso la tramitación y la posterior resolución del mismo

como mínimo un tiempo estimado para las tres fases señaladas de un periodo de entre seis y doce meses a partir de su inicio ese periodo nosotros no lo controlamos y usted tampoco y a todos nos gustaría

precisamente porque nos preocupa como creo que preocupa al conjunto de esta cámara los abusos patronales que se pueden producir

en la contratación porque nos preocupa la precariedad

contratos de trabajo porque nos preocupa el incremento de la desigualdad porque nos preocupa que haya ciudadanos de segunda clase en este país

por todo ello nosotros estamos haciendo lo que está en nuestras manos para que no falten inspectores a los que puedan acudir aquellos que realmente necesitan porque se sienten claramente indefendidos ante situaciones de abuso que todos bien conocemos eskerrik asko

en cambio la prioridad que el artículo cuestionado de la ordenanza reconoce al euskera en las comunicaciones bilingües no vulnera el estatus lingüístico de los castellanoparlantes ya que tal prioridad presupone el uso de las dos lenguas oficiales en la comunidad autónoma y por lo tanto debe ser valorada como una medida de fomento de su propia lengua

egun on guztioi señora consejera

por unanimidad esta cámara instó al gobierno a reformular el sistema de acreditación oficial del conocimiento del euskera pidió

analizara la orientación y los contenidos actuales de las pruebas de acreditación oficial

del euskera ega y otras valorara los resultados

sus causas pedimos algo más acordamos que la comisión de seguimiento de convalidaciones propusiera aquellas mejoras

y las funciones a desempeñar y para favorecer la extensión del uso social del euskera dichas propuestas y conclusiones las queríamos conocer en el parlamento vasco ha pasado el plazo señora y no tenemos conocimiento del resultado de ese trabajo cuándo por tanto va a dar a conocer el gobierno vasco al parlamento vasco
esas propuestas de mejora de los sistemas de acreditación oficial del euskera nada más muchas gracias eskerrik asko celaá anderea erantzuteko uriarte anderea

sí señora uriarte yo le pediría que fuera un poco más precisa en la réplica en su turno de réplica porque ciertamente hay muchas personas que dependen

que no son tan substantivas para la vida de las personas es decir un claro problema de desajuste los resultados del ega son frustrantes para las personas en relación al euskera

contiene exigencias filológicas que si bien son absolutamente coherentes para un puesto de traductor o un puesto de profesor de euskera no lo son tanto para ocupar un puesto en la administración pública vasca y la gente se la juega se la juega en el puesto de trabajo por mor del resultado del ega no solo hablo de euskaldun berris también hablo de euskaldun zaharras por tanto esto tiene prisa

precisamente en este debate la posición que mantuvo el grupo que sustenta este gobierno era la de

es decir primero ustedes pasaron de un escándalo por lo que se pedía pasaron a afirmar que realmente no hacía falta y

ya estaban trabajando en esa materia incluso cuando los demás insistimos en poner cuatro meses hubo

de su grupo o de su gobierno que afirmaban que con tres meses era suficiente yo

conozco la complejidad del tema es decir que no quiero de ninguna de las maneras aminorar cuál es el orden de la tarea pero lo que le reclamo

por lo tanto le pido un poco más de precisión en relación a la fecha en la cual podremos saber el contenido de sus mejoras en relación al ega y si usted quiere
además a otros sistemas de certificación oficial nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá

helaraziko zaio legebiltzarrari me sorprende que me apremie tanto en esta cuestión ya que no se trata de algo nuevo que se haya dado en esta legislatura

en el dos mil diez setenta y siete coma nueve por ciento en el dos mil once setenta y siete coma ocho por ciento

setenta y ocho por ciento y en relación a los plazos también le recuerdo que usted misma en el texto original de la proposición no de ley que ustedes presentaron en julio de dos mil quince otorgaban un plazo de un año para proponer los cambios que consideraran adecuados

en este ámbito en vez de verter críticas por un trabajo que se realiza adecuadamente eskerrik asko uriarte

ahal bada desagertzeko los criterios que parece que ustedes han utilizado a la hora de diseñar este operativo eran de despliegue disuasorio medidas de contención presencia preventiva y estoy de acuerdo con que esos deben de ser los criterios

de vista y estoy de acuerdo porque no hay otro por eso

que se dé una imagen de que esos criterios en realidad

porque pienso que la alternativa que tal vez puedan traer otros partidos como hemos escuchado anteriormente otros sindicatos o tal vez otros ciudadanos una alternativa

si no funciona la prevención generemos más represión generemos más reacción generemos más determinación en la respuesta empleemos armamento más contundente creemos creemos más

o más violencia y esa es precisamente la alternativa de la que eh bildu quiere huir porque no la considera una alternativa sino que la considera mero caos

la prevención para enfrentar estos disturbios de una manera más eficaz eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

cómo vamos a prevenir me preguntaba lo he dicho antes

y prevenir para evitar desde la educación y también desde la actuación policial eskerrik asko

podía haber sido mucho peor pero también le digo que habrá un margen de mejora un amplio margen de mejora porque siempre lo hay y es en lo que quiero poner el acento porque además ese margen de mejora tiene que venir de de contención de prevención y de disuasión y creo que además porque conecta con un valor que es fundamental que es que aquí en esta sociedad hay una posición de que la sociedad en conjunto rechaza estos comportamientos hemos conocido además consecuencias

al caso cabacas un caso en el que todavía no se han

y del que yo creo además que debemos de extraer lecciones definitivas el caso cabacas nos impulsa a establecer garantías de que aquello no se vuelva a repetir

nuevamente le han reabierto las heridas señora consejera consideramos que no se puede fallar en prevención

no se puede fallar en contención porque si no la alternativa es precisamente oponer violencia a la violencia lo cual nos lleva a la violencia al cuadrado

efectivamente en los incidentes de bilbao del pasado jueves por parte de la ertzaintza hubo previsión hubo decisión y hubo planificación

hubo un número suficiente de ertzainas destinados al plan de seguridad y proporcionalidad en la ejecución del mismo cordón de seguridad desde la frontera a bilbao y también en el regreso

en puntos estratégicos de la ciudad durante todo el día para prevenir y evitar y disuadir posibles incidentes más efectivos de seguridad ciudadana

y también con los servicios de seguridad de los dos clubs en definitiva todos aquellos elementos reforzados para las circunstancias de un partido de alto riesgo para evitar que se produjeran incidentes

y a pie de calle en cada momento y desde el corazón del operativo tratando como he dicho de evitar episodios de desorden público y de violencia atendiendo en cada momento a las incidencias que se podían provocar y lo he dicho ya en la primera intervención y repito

no la ertzaintza va a seguir trabajando por mejorar sus servicios

pero yo me pregunto y me he preguntado en la intervención anterior

para que esa parte minoritaria de la afición

hacer y que tiene que preocuparnos sobre todo guk kirol giroko indarkeriaren aurkako

jasotzean eskatutako babesa ukatu ondoren respuestas por cierto en las que les remitíamos a cinco iniciativas parlamentarias

no obstante da la impresión de que este tema no le interesa demasiado

y ahora vuelve sobre el tema en la exposición de motivos que justifica esta interpelación señala usted que se conocen poco los aspectos entorno a las unidades de gestión clínica y por lo tanto me va a permitir que inicie mi exposición aclarando el concepto y el desarrollo que ha tenido

la gestión clínica es un concepto que surge en la década de los noventa fundamentalmente en los sistemas anglosajones como clinical governance implica sustentar la planificación estratégica de la organización y sus servicios sobre una base científica contrastada

el criterio y la participación de los profesionales en la gestión de los procesos asistenciales por tanto las claves de la gestión clínica son

liderazgo y participación en la gestión asistencial de los profesionales

y cómo hacerlo gestionando el proceso existencial para obtener el mejor resultado posible eredu hori zalantzan jartzen duzunean eta disfuntzioaz eta

prestatutasuna usted que siempre hace bandera de la participación profesional no se entiende bien el recelo que tiene sobre las unidades de gestión clínica en innumerables ocasiones le escucho que osakidetza

gracias a sus profesionales y no gracias al consejero pues bien

participación y autonomía profesional para mejorar los servicios

a mediados de los años noventa y no en mayo del dos mil doce como usted me ha dicho

osasuna zainduz aprobado por este parlamento en mil novecientos noventa y cinco

para mejorar la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos favoreciendo cambios en el comportamiento y la cultura de los profesionales con el objetivo

en la gestión de los recursos la materialización de aquel proyecto se realizó a través de los llamados contratos de gestión clínica contratos que nacen

sea entonces una comarca de atención primaria o un hospital hoy una osi a través de las unidades de gestión clínica los primeros contratos de gestión clínica

fue en atención primaria donde se generalizó en el periodo entre los años mil novecientos noventa y nueve y dos mil cinco donde yo tuve el honor de ser el director de asistencia sanitaria esos contratos anuales establecían los objetivos asistenciales y los compromisos de calidad así como el presupuesto

mota bat egitera lagundu du el objetivo cubierto en buena parte ha sido acercar las culturas clínicas y de gestión para que los profesionales participen

de sus procesos en resumen medicina basada en la evidencia calidad asistencial

y reorganización de los procesos asistenciales abandonando las prácticas

realmente le preocupa esto señora ubera me ha vuelto a repetir hoy que le preocupa sigo pensando que esto pone en duda que sigo pensando que usted pone en duda el compromiso del departamento de salud y de osakidetza con las personas

puedan responder a intereses privados benetan

bat la gestión clínica no es más que un cambio en la forma de organizar y entender el proceso asistencial para que sea liderado por los propios profesionales hace poco se me preguntó en este parlamento por la osi debabarrena y por

entonces su preocupación era si las íbamos a quitar yo contesté que no era el caso pero hoy de sus consideraciones se desprende que su problema y su desconfianza no es con las unidades de gestión clínica es con los médicos sí

y si las lideran los médicos a usted le preocupan

prejuicio profesional últimamente desde su grupo y usted en particular

insinuando cuando no afirmando que utilizan su situación para beneficiarse económicamente invertir en cuestiones tan serias como privatización del sistema o listas de espera

y en la rueda de prensa del lunes llegaron a utilizar la palabra picaresca

y confianza a ellos y al resto de hombres y mujeres que prestan cada día sus servicios en osakidetza como bien ha dicho fue durante la pasada legislatura cuando se regularon

pero previamente los estatutos sociales del ente público

en su artículo dieciséis ya las completaban el acuerdo del consejo de administración plantea que los acuerdos de gestión clínica son el documento suscrito entre el responsable de unidades de gestión clínica y el gerente

al contrato de gestión clínica que se establece entre el servicio y la gerencia determina también los órganos de gestión de las propias unidades como puede observar el desarrollo de la gestión clínica en osakidetza no es nada nuevo

sino que viene de más atrás y desde luego no tiene ninguna relación temporal en su desarrollo

organizaciones sanitarias integradas las unidades de gestión clínica

sino que son una fase más del desarrollo organizativo de los centros

ha sido paralelo al auge de la gestión clínica también en otras comunidades además como

como ve se trata de un concepto de gestión ampliamente desplegado

con el borrador del proyecto del real decreto estatal las unidades de gestión clínica constituyen un elemento de gestión que únicamente se pondrán en marcha

y de conformidad con las medidas que cada una de ellas decida incorporar en su normativa autonómica no obstante nuestro criterio expresado

es que no necesitamos una normativa estatal teniendo en cuenta

organizativa y de gestión por lo que su competencia entendemos nos compete en exclusiva

tiene ningún incentivo económico para ninguno de los profesionales que participan de ninguna de las categorías porque efectivamente el incentivo económico está en el sueldo estamos convencidos del compromiso del conjunto de colectivos profesionales

estamos convencidos de que tenemos un sistema sanitario de calidad

y esto no es más que una herramienta más que ponemos a disposición de los centros donde se estima oportuno eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

ubera andrea desde la tranquilidad que me da ver cómo reconoce en esta tribuna lo que dijo el lunes

merecen respeto y son honrados desde la tranquilidad que me da escucharlo

mire lo que tiene que hacer es quitarse la venda la comunidad euskadi

público de calidad que hemos construido entre muchas personas entre muchas personas fundamentalmente

y que probablemente es la institución pública más valorada por los ciudadanos y además tiene

yo le aconsejo que se quite los prejuicios

con los ojos abiertos para que escuche como hacemos muchos actos

pues fallamos mucho pero mucho de muchísimo que es poco porque la mayor parte sale bien y hay ejemplos

no es porque es un buen servicio tiene grandes profesionales los sucesivos gobiernos

de medios y además es la empresa más grande pública o privada que tiene euskadi

yo creo que lo comprende habla usted en la intervención de que hay dudas de si porque sea una unidad de gestión clínica obtienen antes un medicamente o no increíble habla usted

increíble habla usted de puerta entrada a la privatización increíble falta de control público habla de dinámica preocupante

con la salud demagogia señora ubera demagogia nada más lejos de la realidad demagogia

de regímenes anteriores acérquese al sistema sanitario y vea lo que hay bien

en las unidades de gestión clínica porque entendemos que el componente de voluntariedad por parte de los equipos es muy muy importante por lo tanto de veinte organizaciones de servicios que hay en osakidetza solamente ocho

insisto no soy capaz de imaginar a qué intereses privados se refiere más allá del legítimo orgullo profesional de las personas que están participando en las unidades de gestión clínica con la clara intención de mejorar los resultados asistenciales y en consecuencia

y el de la organización para la que trabajan osakidetzako profesionalen helburua hau da emandako laguntzaren emaitzak hobetzea bai eta lanbidean duten prestigioa eta lan egiten duten erakundearena ha vuelto a decir hoy aquí como dijo en la rueda de prensa que los profesionales que trabajan en la pública y en la privada mire la realidad es que a usted no le preocupa que un cocinero de plantilla de osakidetza tenga un bar por la tarde pero sí le preocupa que un medico que trabaja de ocho a tres

con su profesión a mí no me preocupa porque es la manera de tener también a muchos profesionales muy buenos que no dedican su tiempo

yo lo que les exijo es separar la pública de la privada actuar

en el servicio de salud como si fuera suyo y dar resultados en salud esa es mi preocupación y a eso me dedico y lo suyo prejuicio prejuicio

vamos a gestionar contando con todos los profesionales sabemos que la asistencia sanitaria es un trabajo en equipo que todas las categorías son indispensables para el resultado existencial y que los médicos y las médicas de osakidetza son profesionales muy comprometidos tan comprometidos como los demás

defendemos el sistema sanitario público defendemos a sus profesionales y sobre todo trabajamos para las personas pertsonak helburu andrea

hoy no venimos aquí a hablar del hospital de mendaro que ya sabemos que no le gusta

y tampoco vamos a hablar del contenido del real decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince que ya sabemos que a usted no le gusta tampoco le gusta el colectivo de enfermeras

ya asumidas y perfectamente cumplidas tampoco les gustan a los sindicatos tampoco le gusta el parlamento que ya se ha pronunciado en contra

en diferentes ocasiones su intención de recurrir este decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince por cierto ya le hemos pedido desde el grupo parlamentario

de información documentada una copia de esta documentación referida al recurso

entre ellas el colectivo de enfermería y sus representantes sindicales de hecho ya sabemos que han recurrido otros antes que usted ha recurrido la mesa general de la profesión de enfermería

y seguro que a estas alturas de hoy han recurrido ya otros muchos pero usted

y además de anunciar el recurso ha enviado tanto

una carta en la que les informa de que no existe transitoriamente la obligación de cumplir este decreto y que de presentarse algún problema

que va a responder de cualquier responsabilidad civil que se pueda incurrir al incumplir el real decreto

si todo es correcto no es necesaria una póliza de responsabilidad civil

presionando a los colegios de enfermería y a sus directivos para que no informen a su colectivo de colegiados sobre sus obligaciones jurídicas porque son contrarias

según usted el colectivo de enfermería ya hemos dicho no tiene por qué cumplir este real decreto pero claro la profesión de enfermería en euskadi

y qué pasa con el sector privado les va a mandar también usted una carta diciendo que no tienen que cumplir y qué pasa con los que trabajan en las mutuas y

tampoco tienen que cumplir les va a mandar usted una carta asegurándoles que pueden hacer eso y qué pasa con las enfermeras de salud escolar por eso le preguntamos señor consejero considera que hay obligación de cumplir el real decreto en euskadi

considera el consejero que debe de cumplir también

que le decía que utilice todos los medios legales y normativos con el fin de que la actividad de la enfermería siga teniendo la seguridad jurídica que ha tenido y su práctica profesional se desarrolle con todas las garantías sin que enfermeras y enfermeros se vean obligados a adoptar conductas que les pongan en riesgo tanto a nivel personal como profesional

me sorprende que siempre ha sido muy prudente y que pone por delante la seguridad jurídica antes de tomar ninguna decisión

para resolver la compensación al copago siempre con la seguridad jurídica por delante o también

en este caso quiero creer que también cuenta con un informe jurídico que le permite

decir que no hace falta cumplir el real decreto pero

de la misma autoridad para informarnos de qué decretos podemos cumplir y cuáles no podemos cumplir porque a mí personalmente me

y preguntarle a ver si tengo derecho a no cumplir el código de circulación le podemos pedir eso a la consejera de interior y no me salga diciendo que hay otros servicios de salud que no tienen soluciones o que servicios dirigidos por socialistas tampoco sabe a mí me gustaría que no me preguntara usted por la paz del mundo porque eso también me preocupa pero no puedo dedicar a ello mi responsabilidad y preocupación es euskadi

en fin esperamos que nos diga cómo va a resolver el problema que se presenta

que se prestan a la población en euskadi nada más y muchas gracias eskerrik asko

no sabe lo que celebro escucharle que le preocupa euskadi creí que íbamos a salir hoy de aquí sin ningún acuerdo

de la indicación uso y autorización de medicamentos por parte de los enfermeros porque así se llama con fecha treinta de julio de dos mil trece el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad

con el consejo general de enfermería de españa y el sindicato de enfermería en boca de su secretario general también de españa acuerdo que incluía entre otros aspecto aspectos de ordenación profesional competencia de las comunidades

uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los enfermeros se acordó su desarrollo reglamentario a través de un texto concreto

emitida por el ministerio y que correspondería igualmente al ministerio resolver

y productos sanitarios con sujeción al procedimiento que se establecía en dicho acuerdo

y definida para incorporar al futuro texto del proyecto del real decreto

de dicho acuerdo y con el beneplácito del consejo general del colegio de enfermería

fuimos excluidas las comunidades entre ellas euskadi el satse que en el año dos mil trece nos acusaba de recortes en euskadi firmaba con rajoy con fecha veintiséis de marzo de dos mil quince el proyecto del real decreto pasó por el consejo

y opinión favorable como consta en el acta del consejo el veintitrés de julio el consejo de estado emitió también un dictamen favorable al mismo

el consejo de ministros aprobó un texto de real decreto con una modificación sustancial

y respecto a lo informado favorablemente por el consejo de estado

y tras la celebración de las elecciones generales se publicó en el boletín oficial del estado

este consejero de salud desde la presentación del borrador en el consejo interterritorial se ha manifestado siempre a favor de las competencias de enfermería y entre ellas de la prescripción de determinados medicamentos y con este objetivo

tanto con los colegios de médicos como con los colegios de enfermería de euskadi le voy a recordar las fechas para que vea de cuándo venimos veinte de abril del dos mil quince con los colegios de médicos cuatro de mayo con los colegios de enfermería seis de noviembre con los colegios de enfermería nueve de noviembre

a los que han seguido reuniones posteriormente a la aprobación de este real decreto horrenbestez ekimenaren justifikazioan

como usted señala señora roncal se aprobó el veintitrés de octubre del dos mil quince hace cinco meses y esta circunstancia

hoy aquí y ahora dice usted señora roncal en la justificación de su interpelación de este real decreto que es de obligado cumplimiento mire no podemos estar más de acuerdo este gobierno ha defendido que este real decreto es de obligado cumplimiento e incluso pensamos

e incluso que son también de obligado cumplimiento para los grupos parlamentarios

que su grupo ha presentado ha apoyado esta legislatura en esta cámara y el grado de cumplimiento de la legalidad de muchas de ellas

su grupo ha votado favorablemente una proposición no de ley

sin respetar la tasa de reposición aplicable que por cierto inventó el gobierno del señor zapatero y que actualmente viene definida por una ley del estado

estos son pequeños detalles sin importancia porque a fin de cuentas

y yo sí el real decreto de prescripción de enfermeras es de obligado cumplimiento es tan de obligado cumplimiento como la no universalidad a la atención sanitaria de las personas inmigrantes como el copago farmacéutico en pensionistas y desde luego de tan obligado cumplimiento como el estatuto de autonomía de gernika ley esta última que viene incumpliéndose desde hace treinta y cinco años con el beneplácito de unos

el departamento de salud y el gobierno vasco se han posicionado en contra del real decreto de prescripción de enfermería

no son propósitos son hechos concretos

dos de febrero el consejo de gobierno acordó autorizar la interposición del recurso contencioso administrativo contra el real decreto interposición que se efectuó la semana pasada y además solicitando medidas cautelares

se lo pediré gustosamente al departamento de justicia y función pública para dárselo porque debería saber el departamento de justicia el que establece los recursos al contencioso administrativo del tribunal superior además

de nuestra firma de posición el grupo parlamentario del partido nacionalista vasco

la semana pasada en madrid me dice usted también que este consejero envió una comunicación al colectivo de enfermería que presta sus servicios

se equivoca señora roncal se equivoca supongo que es que

este consejero el treinta de diciembre una semana después de la publicación del real decreto

a todas las direcciones de los centros las direcciones señora roncal

públicos privados mutuas y los centros sociosanitarios señora roncal uno ya peina canas eh para que todo el personal médicos enfermeros enfermeras y mandos supieran cómo no dejar de aplicar el real decreto sino interpretar su aplicación correctamente

los profesionales no han recibido pues instrucciones contradictorias sino instrucciones concretas

jurídico y celebro que se sume usted a este reconocimiento y que se dé cuenta de la importancia del colectivo de enfermería

las iniciativas que ha hecho a favor del colectivo de enfermería antes de este real decreto porque yo sí me he molestado en repasarlas y créame

y volviendo a su soflama alarmista en relación a los riesgos de responsabilidad civil y penal que corren los enfermeros y enfermeras después de once semanas desde la entrada en vigor del real decreto no conocemos ninguna demanda judicial

que realiza el personal de enfermería diariamente tanto en euskadi como en el estado pero nosotros no estamos en el real decreto en contra solo del artículo tres punto dos estamos en contra del real decreto

estamos en contra de que los protocolos asistenciales se elaboren y sean validados por la dirección general de salud pública calidad e innovación del ministerio porque de acuerdo al estatuto de autonomía son competencias nuestras en esta materia

para prescribir enfermeras que tienen el título de grado que han hecho

y estamos también en contra de que enfermeras que tienen un postgrado y por lo tanto han hecho

o cuatro más dos de especialización como las matronas tengan que hacer un curso

y estamos en contra de que alguien quiera convertir la capacitación en un negocio de formación continuada como ven nuestra posición al real decreto de prescripción enfermera va más allá de un artículo

no ha empezado hoy señora roncal lleva ya muchos meses lo que llevamos trabajando en esto con el ministerio con los colegios con los colegios de médicos con los colegios de enfermera y con las organizaciones de osakidetza y lo vuelvo a repetir estamos

estamos a favor de la prescripción de determinados fármacos y bajo determinadas condiciones de protocolización y sobre todo de trabajo en equipo eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

por la información planteada por la cordialidad con la que nos responde siempre que no tiene precio le agradezco profundamente eso segundo se equivoca usted o le falla un poquito la memoria mire en el último pleno de control del periodo anterior de sesiones yo

acerca de la situación del rol de las enfermeras en euskadi

de esa interpelación le hice una moción consecuencia a interpelación que se sustanció el cuatro de febrero primer pleno de este periodo de sesiones por tanto no diga usted que no tenemos preocupación por la situación de la enfermera o del colectivo de la enfermería lo hemos hecho incluso antes de que se publicara el real decreto novecientos cincuenta y cuatro del dos mil quince

la interpelación como usted recuerda muy bien fue el último pleno de control de diciembre así que cuando usted recrimina cosas por lo menos apóyese en datos adecuados y correctos no me hable de cómo se había negociado el decreto que luego no se negoció

de lo que podía haber sido y no fue lo que es es el real decreto aprobado que impide a las enfermeras

medicamentos en el desarrollo de su profesión en aquellas partes que ellas trabajan autónomamente como usted mismo ha señalado matronas en el proceso del parto curas a heridos úlceras por presión quemados

actuaciones que hace la enfermera sobre todo la de atención primaria sobre todo la de atención primaria y que venía haciéndolo

sin amparo legal pero lo venía haciendo este real decreto en lugar de como usted ha señalado todos aquellos acuerdos que luego se frustraron este real decreto les viene a retirar todas esas competencias y no os lo digo yo es que lo dice el abogado del estado el abogado del estado como usted sabe

a un recurso de otras personas afectadas por este real decreto señala que la actuación de las enfermeras prescribiendo medicamentos para los cuales no tenían competencia legal suponía un ilícito penal continuado denominado intrusismo

no hay póliza de responsabilidad civil que lo soporte por lo menos

aseguradora que tenía osakidetza hasta hace muy poco ahora no sabemos quién tiene pero hasta hace muy poco zurich

ha dicho según petición de información por otros colectivos que también tienen póliza de responsabilidad civil contratado con zurich que no responde con una póliza de

como usted sabe muy bien la responsabilidad penal es personal e individual y no

solo con dinero de una responsabilidad civil

por tanto el incumplimiento del real decreto que usted está poniendo en posición a las enfermeras

le está poniendo en posición de ilegalidad por obligarles su carta

que se puede incumplir el real decreto que ya tiene esa póliza de responsabilidad civil

si todo lo que hacen es correcto si todo lo que hacen es correcto no les señale que existe eso termino diciendo que desde luego

y le vuelvo a decir claro ya sabemos todos efectivamente

el colectivo de enfermeras lo hace muy bien el colectivo de médicos también lo hace muy bien pero usted sabe que hay un grupo de médicos

que está dispuesto a denunciar a cualquier enfermera a la que vea actuando en el sentido de que usted dice que pueden actuar sí no se haga de nuevas

que aplauden con las orejas este real decreto así que ya sabe usted que tiene una moción para que modifique su conducta eskerrik asko roncal andrea

no el tono el tono cada uno utiliza el que puede

que en el último pleno del pasado periodo de sesiones o sea

sobre profesionales de enfermería yo le voy a recordar que esta legislatura empezó el diecisiete de diciembre del dos mil doce luego tres años después a usted le preocupó algo de la enfermería pues hombre que quiere que le diga

por otro lado no tergiverse usted las cosas y vuelva usted a la

sobre la osi debabarrena la cual mezclaba con la prescripción de enfermería yo lo recuerdo ya muy bien con la prescripción de enfermería por lo tanto estábamos mezclando churras con merinas

o estaba más ya con la prescripción de enfermería porque ya había sido aprobado por el consejo de gobierno

nosotros no es que no tengamos preocupación por el tema de la enfermería llevamos trabajándolo años ahora si esta comunidad ha llegado a este consejero sin regular la prescripción de enfermería esperando al estado ha sido

entre ellas la de ustedes que no como en andalucía regularon aquí se llegó sin ninguna regulación entonces pues mire celebro ahora todas sus preocupaciones pero hechos hechos

penal como usted bien ha dicho es individual ahora y siempre en enfermería

en todos y eso no ha cambiado ni con este real decreto ni ningún otro nuestra responsabilidad

y seguir ofreciendo un servicio de calidad a las personas por encima de intereses corporativos de unos y otros y de torpezas de terceros que regulan mal lo que era un gran beneficio habiéndolo hecho bien y esté usted segura de que será rectificado y esté usted segura de que será rectificado por otro lado

identifica ya y estima la adecuación de protocolos en su artículo y establece que en el ejercicio profesional se tenderá a la unificación de criterios de actuación basándose en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica

y científica y los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa como guías de decisión por los profesionales es decir tenemos protocolos señora roncal en cuya elaboración han participado profesionales cualificados

en base a evidencias científicas y que periódicamente son sometidos a evaluación la ausencia de protocolos y guías de práctica clínica elaborados y aprobados conforme a los criterios

dejen de estar en vigor el real decreto no ha derogado la ley cuarenta y cuatro barra dos mil trece y se lo quiero dejar claro y como usted bien sabe yo no soy jurídico pero todas las comunicaciones que hemos hecho están amparadas en informes jurídicos no me cansaré de repetirlo el real decreto es totalmente desafortunado pero señoría

ni se dan instrucciones contradictorias ni existen más riesgos de incurrir en responsabilidad civil y penal que antes de su aprobación disponemos de los resortes legales necesarios para que a pesar de la situación generada

sigamos prestando un buen servicio con calidad y seguridad para los pacientes y también con seguridad para las y los profesionales

y el ejercicio de las competencias profesionales dentro de la legalidad señora roncal dentro de la legalidad por esta razón más allá del respeto a las reivindicaciones

en las organizaciones sanitarias ni entre los y las profesionales la solución vendrá del abordaje de un nuevo proceso negociador

que cuente las competencias de las comunidades autónomas que cuente con consenso profesional

médicos y de enfermería este es nuestro criterio y nuestro empeño

eskerrik asko mahaiburu andrea señor consejero venimos a hacerle una pregunta acerca de la situación del hospital onkologiko

en este parlamento analizamos la situación de la oncología en gipuzkoa y aprobamos la incorporación del instituto onkologiko al servicio público

no estábamos pensando en mejorar el balance de la fundación kutxa estábamos pensando en la oferta oncológica que tenía que hacer

el departamento de salud a la ciudadanía guipuzcoana estábamos pensando que era mucho más eficiente y mucho más adecuado

de oncología que planificara decidiera organizara y pusiera cuantos recursos fueran necesarios para conseguir la mejor oferta posible de oncología en gipuzkoa a pesar de que se aprobó en el parlamento

dicho acuerdo de incorporación a la pública usted no consideró asumir eso y

diciendo que el concierto iba a resolver

no solo iba a conseguir un único servicio aunque hubiera dos titularidades diferentes iba a hacer un proceso de fusión

de tal manera que hubiera pues como si fuera un único servicio de oncología repartido en dos sedes y que se repartieran el trabajo compartieran

vale tiene usted un representante en el consejo de administración del onkologiko qué ha pasado tres años después

bueno vamos a empezar diciendo que ya hay una anomalía porque el concierto les financia o una cantidad independientemente del servicio que presten da igual que presenten una actividad de cien que de noventa usted no va a pagar más que noventa que es lo que tiene acordado por lo tanto un gran estímulo para que el onkologiko cada vez asuma más tarea claro

más pierde primer error segundo tres años después le hemos preguntado acerca de la actividad que tiene hoy el onkologiko

menos pacientes en los últimos tres años oiga dónde está bueno y de fusión y de integración funcional

y de compartir historias clínicas ni siquiera tienen eso eso que usted dice que osabide global no es de osakidetza es de los ciudadanos pues por qué no tiene osabide global el onkologiko por qué no

cuál es el problema que usted está considerando por el cual no se puede realizar sus compromisos eskerrik asko

debo reconocerle que piensa usted mejor que lee no sé para qué baja papeles si lo hace mejor sin papeles voy a comenzar mi intervención diciéndole algo que hemos dicho muchas veces

gracias al concierto sanitario que el diecinueve de diciembre del dos mil trece firmamos el departamento de salud y la fundación onkologikoa se han sentado las bases para una atención oncológica integral en gipuzkoa y se ha garantizado

asistencial y económica del centro y de sus trabajadores y trabajadoras cuando asumimos la responsabilidad de gestionar el departamento de salud

y económica muy preocupante en onkologikoa

durante tres años consecutivos no en este periodo señora roncal

en el anterior con el objetivo de colocar al centro en inseguridad y debilidad esta incertidumbre se ha solventado con la firma del concierto antes mencionado me pregunta por qué el departamento de salud está disminuyendo la utilización de onkologikoa

o ha leído mal los datos o los ha interpretado erróneamente

que no se pueden sumar mamografías quimioterapias radioterapias estudios de medicina nuclear hospitalizaciones y consultas de palote en palote evidentemente hay cosas que suben y hay cosas que bajan en función

nos estamos preocupando le tengo que contestar que el nivel de utilización de los servicios de este centro con variaciones puntuales no ha disminuido a lo largo de esta legislatura y también le tengo que contestar

que efectivamente se está poniendo osabide global muy tarde y se tenía que haber puesto hace tiempo en este momento se está trabajando y antes del término de esta legislatura onkologikoa

compartirán datos porque se está trabajando ya en la aplicación para hacerlo eskerrik asko darpón jauna

empiezo por excusarme porque ahora tengo papel seguramente lo voy a hacer peor

porque con los papeles la verdad es que el tono y la cordialidad no son efectivamente maravillosos pero eso es como lo del escorpión según usted nos dice está en su naturaleza en fin hoy hablamos no de pasado no de lo que hicieron otros sino de su responsabilidad de lo que está haciendo usted

asegúrese de que la integración funcional del onkologiko avanza

así que asegúrese de que se trabaja en pro de la integración funcional

me dedico a medicina usted sabe que el parlamento controla y legisla que la responsabilidad del gobierno es gobernar

presupuesto que no ha abordado en ninguno de los ejercicios

la continuidad del centro en régimen de concierto y del que ustedes no hicieron ninguna objeción al respecto

concretamente cuarenta señora roncal pero cuando llega el momento de la verdad ustedes no defienden un cambio de situación

ni la legislatura pasada intentaron publicitarlo ni han hecho ninguna enmienda al presupuesto en este sentido ni el representante que también el partido socialista de euskadi en el patronato

algo así en el patronato a nosotros lo que nos preocupa es la atención oncológica global sin florituras señora roncal los pacientes oncológicos tanto de gipuzkoa como de álava y bizkaia están perfectamente atendidos

de la red asistencial ulertzen dut oso gogorra dela datuak

por último partiendo de la base de que onkologikoa es un centro privado

que usted después de cuarenta iniciativas en este parlamento entre su grupo y otro

qué quieren y cuáles son sus proyectos para el futuro de euskadi eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua

eguerdi on gracias señora presidenta

con la última interpelación y tenemos a todo el personal ansioso por que seamos breves

dudo mucho que seamos tanto divertidos como la intervención anterior

el gobierno vasco en un alarde obsequioso

y por su cuenta y riesgo al margen de esta cámara nos sorprendió el pasado mes de enero con un proyecto propio privativo para soterrar el tren de alta velocidad en bilbao sobre el

o en las pantallas en su versión digital quedaba

la verdad más bonito más barato

demasiado bueno y demasiado fácil para ser cierto y para ser viable dónde hay que firmar si fuera así desde luego

hay que ser muy ingenua para no saber que la clave de todo el debate

es una cuestión de dinero y de tiempo de momento

parlamentarias y políticas ojalá no pero de momento de tiempo y dinero si fuera por infografías y maquetas estaría todo resuelto pero no es así señora oregi el partido popular de bilbao

queremos que el tren de alta velocidad pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y también queremos

digo para que quede claro de entrada y si se soterra la estación en consecuencia contaríamos con

y hay muchos motivos y muy importantes que en el ayuntamiento saben de sobra

y convendría que se soterrara la entrada de la alta velocidad en bilbao sé de lo que hablo

el soterramiento de la alta velocidad en bilbao es un proyecto estratégico de ciudad y como tal habría que abordarlo como un proyecto de ciudad

es imprescindible y que el partido nacionalista vasco y sus gobiernos duden en aportar dinero para este proyecto créanme que es

no se entiende mire señora oregi me consta de su razonable sintonía

lealtad y ánimo constructivo es más fácil avanzar en el proyecto por eso le animaría a que le dijera a otros compañeros y responsables de gobiernos que

que se han abierto pasos estos últimos días con este asunto

aunque no lo reconozca creo que le inspira más confianza un gobierno de españa del partido popular

con la alta velocidad en euskadi y con su llegada a bilbao además hay razones para ello no solo una cuestión de predisposición mía hay razones para ello usted es perfectamente consciente

con este gobierno del partido popular y con esta ministra en el tren de alta velocidad lo que se ha invertido en los últimos cuatro años no tiene parangón ni comparación con lo que pasó anteriormente

no tengo para olvidar el acto organizado por el ministro josé blanco

que eran quienes gobernaban entonces de aquella presentación a ahora yo creo que estamos mucho mejor

vi la noticia en el periódico la de su consigo mismo y su equipo proyecto

pensé dos cosas la primera cómo es posible que el ayuntamiento de bilbao principal interesado y beneficiado con este asunto parezca un convidado de piedra dónde está el ayuntamiento y segundo cuánta razón tiene el titular de la noticia el gobierno vasco quiere el tav y mucho más para bilbao

más para bilbao es lo que fundamentalmente nos compete a nosotros

y está en ello con unos compromisos claros e inequívocos pero el mucho más es cosa de vascos de vizcaínos de bilbaínos

ni de transporte ni de intermodalidad ni de desplazamientos ni de velocidad que por supuesto es también

una apuesta urbanística social de futuro de oportunidad estratégica por eso

de país vasco de este parlamento también y no lo quieren asumir como tal

desde el partido popular el proyecto que ustedes manejan adolece de insuficiencias técnicas económicas cronológicas se lo han dicho por escrito su proyecto ha sido analizado y evaluado

y cuanto menos este informe debiera bastar para reconsiderar el planteamiento del gobierno vasco el informe justifica además de forma pormenorizada todos los problemas

pero incluso salvadas las cuestiones técnicas haría usted bien en reconocer en este parlamento que sin poner más dinero y esperar más tiempo es imposible contar con una estación soterrada en bilbao

si es algo prioritario para el país pongámonos de acuerdo entre vascos y entre bilbaínos y bilbaínas y actuemos en consecuencia colaborando política y económicamente

se financie el soterramiento del tren de alta velocidad en bilbao lo que no sé es si ustedes están dispuestos a que con sus impuestos se soterre el tren de alta velocidad si no es así no nos cuenten historias que pierden credibilidad señora oregi en menos de un mes estoy viendo escenificar a dirigentes y responsables institucionales del pnv un papel que no cuela cuando a instancias del partido popular en el ayuntamiento de bilbao se debate

para días más tarde en un desayuno informativo con todos

ese compromiso presupuestario y eleva el tono algo inusual en él que no lo suele hacer nunca para camuflar esa falta de compromiso

no lo entiendo sinceramente por eso le interpelo señora consejera para que me responda qué propósitos tiene el gobierno vasco para colaborar técnica política y presupuestariamente

a su llegada al centro de bilbao gracias eskerrik asko ruiz andrea jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburu legebiltzarkideok el año pasado en el año dos mil quince

la propuesta de entrada del tren de alta velocidad a esa ciudad desde el primer momento aquella propuesta que nos presentaban no nos encajaba la propuesta

valorada en cerca de ochenta millónes de euros en la que sencillamente los trenes siguen llegando a abando en superficie es además una propuesta contraria a la presentada por el ministerio de fomento en el año dos mil diez en el que ya se contemplaba una solución soterrada que además de tener diversas ventajas funcionales posibilitaba

en definitiva que con la propuesta que nos hacía el ministerio de fomento en septiembre de dos mil quince habíamos ido

para los intereses de euskadi y de bilbao la propuesta de adif como digo es una propuesta provisional de acceso hasta abando

en superficie mediante la instalación de un tercer hilo desde la boca sur del túnel de cantalojas

tal y como se refleja en el estudio informativo de la nueva red ferroviaria en el país vasco tramo basauri bilbao

mantienen una playa de vías compuesta por trece vías en superficie trece vías en superficie ocho de alta velocidad y cinco de cercanías

y además muchos problemas para bilbao el peligro que lo provisional se convierta en definitivo nadie va a venir de nuevo aquí a darle una vuelta a esa provisionalidad quién nos asegura que vamos a tener más inversiones para deshacer lo que se está haciendo y gastando ochenta millónes de euros

además mantiene las vías en superficie por tanto no liberamos suelos necesarios para desahogar toda esa zona impide la comunicación trasversal entre las diferentes calles la calle bailén y hurtado de amezaga perpetúa la mala comunicación de bilbao la vieja con el centro de bilbao ahonda en la brecha existente en la ciudad en esa zona

ochenta millónes de euros que si de nuevo se viene a hacer la solución definitiva irían directamente a la basura ochenta millónes que no servirían para nada en la definición de la solución definitiva por eso el gobierno este gobierno y el departamento que dirijo dijimos que no y como tenemos y como también usted sabe y reconoce una relación de trabajo leal y fructífera con el ministerio de fomento a lo largo de toda esta legislatura

y lo que nos plantean es que tiene que estar terminada la estación en el año dos mil diecinueve por el famoso dos mil diecinueve aunque

que los túneles de acceso entre basauri y la peña es muy improbable que estén para esa fecha y que además

está cada vez más lejana y cada vez más improbable además para proponer la solución provisional fomento también alega problemas de disponibilidad presupuestaria de lo que podemos entender en los tiempos que nos toca vivir de acuerdo con todo esto

manifestaba fomento quedamos de común acuerdo en seguir colaborando dentro del convenio de colaboración existente con ellos con el gobierno estatal entre el gobierno y nosotros en mejorar la entrada de bilbao y en hacer un trabajo conjunto técnico entre las dos administraciones y en eso estamos

el compromiso fue que para antes en aquella misma reunión en septiembre pusimos encima de la mesa una serie de planteamientos compartidos porque estaba el alcalde de bilbao conmigo en la mesa sentado y con la señora pastor enfrente pusimos una serie

fue de estudiarlos y de presentarnos y de

antes de fin de año dos mil quince en el entretanto supongo que todos recordamos que el veinte de diciembre

antes de esas elecciones no quisimos decir nada

venía el final del año dos mil quince vencía el compromiso que habían adquirido con nosotros

la solución estaba encima de la mesa de fomento y ellos lo sabían la estábamos trabajando no quisimos decir nada públicamente señora ruíz no quisimos decir nada públicamente hasta que venció efectivamente el año dos mil quince

y ante las preguntas y ante la insistencia y ante el lógico interés que toda la ciudadanía de bilbao yo diría de euskadi tienen por esta solución

que radicalmente mejora bilbao expusimos la solución que nosotros habíamos propuesto al ministerio y que el ministerio tenía desde hacía ya unos meses encima de la mesa

la propuesta que hace el gobierno vasco que yo creo que también la conocen consiste en una nueva estación soterrada con vías en dos niveles en el nivel uno si sitúan las vías de feve y las de cercanías renfe

se sitúan las vías de alta velocidad la funcionalidad ferroviaria de la nueva estación en situación definitiva es similar

lo que cabe arriba cabe abajo es bastante fácil de entender

la propuesta del gobierno vasco consigue rebajar la cota de urbanización respecto a la propuesta del ministerio nos permite la

permite abrir nuevos viales trasversales a la parcela y elimina la brecha que existía hasta ahora

al centralizarse el acceso de viajeros en un solo edificio y en la propuesta

hay dos edificios independientes con vestíbulos diferentes y eso no simplifica precisamente los tránsitos

lo que planteamos son distintas fases planteamos una intervención por fases porque somos conscientes de los problemas presupuestarios que estamos viviendo las administraciones en estos tiempos hacemos

las cargas financieras asociadas a la operación y de esta forma ya en la primera fase

a partir de ahí con unos plazos adicionales se iría haciendo el resto de actuaciones

pero además la propuesta del gobierno vasco incluye mejoras técnicas que permiten simplificar varios aspectos de construcción de la infraestructura quedándonos muy por debajo de los cuatrocientos cincuenta millónes que tenía encima de la mesa el ministerio de fomento y que tiene

solución definitiva cuatrocientos cincuenta millónes son la solución definitiva que se plantea desde fomento nosotros estamos por debajo de eso y hacemos una propuesta realista clara técnicamente solvente

de esta forma señora ruíz porque

mucho mejor con planos con esquemas con

cómo queda la integración urbana cuál es la solución de unos cuál es la solución de otros

para los miembros de la comisión porque usted me había pedido una comparecencia en comisión para el martes por la tarde cosa que había preparado y digo con mucho cariño mucha ilusión y con todo lujo de detalles gráficos para explicarles esta solución y los trabajos

con el ministerio y que seguimos trabajando con el ministerio porque el ministerio

bien de cómo está la última hora de las cosas como digo tenía todo preparado y usted

sin previo aviso bueno pues me puso esta interpelación

la comparecencia lo cual me dio mucha pena

para hacer las cosas como ustedes nos las pidan en cualquier caso con permiso de la presidenta me gustaría dejar a disposición de sus señorías

el documento gráfico donde se ven todas las soluciones de entrada a bilbao porque creo que es algo que despierta interés y también en el

para que pueda ser distribuido a todos los que estén interesados por comparar cuáles son las soluciones

sí señora oregi la comparecencia la he pospuesto no la he retirado

en segundo lugar lo que hubiera sido realmente

esa documentación que ahora deja aquí la hubiera conocido yo en la comisión y no en el periódico

que la propuesta no les encajaba

y se lo he dicho expresamente en mi intervención es que se están replanteando a raíz del informe del ministerio con todos los problemas técnicos de seguridad

de viabilidad es que además es muy pormenorizado no es un informe a la ligera es que concreta y detalla

yo creo que esto tiene que mantenerse a otros niveles de debate y eso es lo que yo no subestimo a los técnicos de

un informe como si tal yo creo que en eso no ha dicho nada

del tema técnico que no es un tema menor es importantísimo siguen ustedes y es la habilidad

que aquí no se comprometen y por eso tendré que hacer una moción para saber si están dispuestos a comprometerse presupuestariamente en el soterramiento

porque en el ayuntamiento de bilbao por lo menos le hemos arrancado no sé si luego ese papel se lo llevará el viento pero se ha arrancado un compromiso por eso me ha sorprendido tanto que el señor aburto

no fuera capaz de hacer alusión a ese compromiso en el pleno del ayuntamiento

ante todo el pnv ahí en el ercilla la cosa cambia yo sinceramente echo de menos

echo de menos un liderazgo por parte del ayuntamiento y del alcalde para conseguir compromiso presupuestario de todas las instituciones incluido el gobierno vasco para financiar el soterramiento y en esa sí estamos todos pero es que ustedes no lo dicen con la misma claridad que lo décimos nosotros

yo con mis impuestos que soy bilbaína quiero pagar parte del soterramiento porque es muy importante para bilbao muy importante a nivel urbanístico a nivel social a nivel estratégico a nivel de ciudad pero ustedes no parece que estén en las mismas eso es lo que les afeo y no reconoce que es una cuestión

y de dinero ya digo y contentos que todavía las cosas están como están y con un gobierno en funciones pero ya no quiero ni pensar

con otros actores políticos dónde va a quedar el soterramiento de la alta velocidad en bilbao dónde va a quedar y mire cuando hablamos de soterramiento

la estación de autobuses y esa solo depende

pero cuando hablamos de soterramiento y de credibilidad y de voluntad política para hacer las cosas

un buen ejemplo de cómo serían ustedes capaces de soterrarlo también

en la villa el tren de alta velocidad insisto vamos a tener que hacer una moción para que nos quede claro

que el gobierno vasco quiere aportar dinero de los impuestos de los vascos y de los bilbaínos para soterrar la alta velocidad porque es un proyecto de país

y tienen que reconocer que para que eso sea así tenemos que colaborar económicamente los vascos y los bilbaínos

y que además eso supone más tiempo y eso no lo dicen en tribuna y no se comprometen ya digo que lo del alcalde el otro día la del ayuntamiento de bilbao pues yo creo que fue casi hasta una encerrona
a ver ustedes que hacen la semana que viene eskerrik asko ruiz anderea denbora agortu zaizu oregi anderea zurea da hitza

incomprensible porque reivindica usted que ha sido concejala del ayuntamiento de bilbao y que

pero la verdad es que me entraban dudas lo pregunté expresamente dije cristina no la conocía a usted la conocí aquí decía cristina viene del ayuntamiento de bilbao verdad sí qué cosa tan raro

en torpedear el proyecto de soterramiento de la entrada del tav en bilbao por qué no lo entendía de verdad que no lo entendía y después de

menos me habla usted de un proyecto propio se sorpresa de chulo aparente idílico me ha llamado ingenua que las cosas técnicas tiene otra seriedad y tal

el proyecto es chulo y aparente comparto con usted de idílico nada es realizable y tampoco es un proyecto propio por sorpresa le digo que estamos trabajando

eso que usted llama todo el rato el informe técnico

nota técnica que no tiene ni firma es una cosa que se llama nota sobre la propuesta del gobierno vasco para la estación de bilbao y fases de ejecución

de diciembre después de eso hemos seguido trabajando y esa nota tiene otra nota técnica del gobierno vasco que dice explicaciones a la nota técnica y eso se solventa en la reuniones técnicas entre adif y ets y van

y van acercando posturas técnicas el veintiséis de enero en el ministerio estuve otra vez con la señora ministra el veintiséis de enero estuvimos las dos con nuestros equipos reunidas por la tarde

o parte de su grupo habían estado por la mañana efectivamente señora llanos la señora ruiz no pero los demás sí estaban por la mañana intentando
conseguir que la ministra a la tarde a mí me dijese que no querían nerea no es tu turno por favor no es tu turno

con eso allí o seguramente estarían hablando de otras cosas y de alta política no lo sé

y que seguimos trabajando y que el ministerio asume que la solución soterrada en bilbao es factible es posible y que si las instituciones vascas con el ayuntamiento de bilbao y el gobierno trabajando de la mano como lo estamos haciendo

el ministerio también lo apoya esto es así por tanto

enterrar la solución de la entrada a bilbao que no soterrar intente usted señora ruiz yo le animo

a que construya es mucho más divertido y mucho más productivo construir que destruir

ayudar que entorpecer

sigue siendo eso una nota técnica también me gustaría saber de dónde salió el encargo a alguien del ministerio para que pusiese en un papel

después de que habían aparecido las noticias que habían aparecido en los periódicos en cualquier caso le pido por favor que no estropee las buenas relaciones que tenemos entre las dos administraciones

ha pasado que estamos en otro momento todos menos usted que no entiendo de verdad por qué se empeña

trabas a una solución que como usted mismo reconoce y su grupo reconoce es mucho mejor para bilbao es factible es posible y además hablamos

competencia del estado español para la que estamos pidiendo menos inversión que la que el propio ministerio tiene planteada de cuatrocientos cincuenta millónes eskerrik asko eskerrik asko